me voy a repetir como el ajo pero como venimos diciendo desde el principio no se trata de que rueden cabezas de cortar cabezas no se trata de buscar culpables ni de amenazas ni de chantajes

no vamos a chantajear se trata de aclarar lo sucedido de investigar

de tomar medidas para que no ocurra otra vez lo mismo en eso nos hemos empecinado desde el principio a pesar de que no se nos entendía y vamos a seguir trabajando

de los grupos parlamentarios miren hacia otro lado a pesar de que se nos pongan continuamente obstáculos para el cambio de modelo de política del personal

de la oposición y no de las oposiciones a pesar de las estrategias comunicativas y políticas del chipirón

sin entrar al fondo de la cuestión entre otras cuestiones porque supone trabajo

y por desgracia estamos acostumbrados a la política del titular y del desprestigio en vez de entrar al fondo de la cuestión en vez de entrar a los contenidos que de momento parece que funciona

behar dugu necesitamos hechos entrar al fondo de la cuestión

sin frivolidades sin frivolidades y fuera de la dinámica electoral que no se utilicen las elecciones para desviar la atención y tampoco se coloque

electoral para esconder la falta de voluntad del gobierno para actuar y para afrontar y para solucionar el tema eskatuko genuke eta eskertuko genuke

este caso ha dejado en evidencia que existen malas prácticas en la administración pública vasca existen élites que funcionan con un

cuestionable cuando no delictivo eso será la fiscalía que tenga que aclararlo existen malas prácticas que a la ciudadanía nos genera

tiene la sensación de que depende a qué árbol te arrimes mejor es la sombra que te cobija

hay indicios que demuestran que esas malas prácticas están más que asentadas

que algunos puestos estaban dados a dedo de que algunos eran juez y parte

hubo delito no lo sabemos le corresponde a la fiscalía decirlo de momento parece que ve indicios hubo

seguro no cabe ninguna duda y eso nos corresponde al parlamento vasco investigarlo y corregirlo
está en nuestras manos eskerrik asko ubera

sailburuak legebiltzarkideok ongi etorria murga anderea desde el grupo popular también le deseamos

de uno de los departamentos más importantes del gobierno vasco redundará en beneficio de todos los vascos pero también le digo y le décimos desde el grupo popular que para ese éxito

un cambio en la gestión en algunos aspectos también relevantes de su departamento como es el que tiene que ver con toda la política de personal y de recursos humanos en su departamento por lo tanto esperemos que los primeros meses de su andadura en su nueva responsabilidad su cometido principal sea dirigido desde luego

propia reorganización de recursos humanos de su departamento quiero empezar esta intervención diciendo que la actuación del grupo popular

ha sido de absoluta responsabilidad rigor y tratando de salvaguardar en todo momento el buen nombre

las preocupaciones de los aspirantes a esta ope estamos hablando

aspirantes personas que se han presentado cuyas expectativas en buena medida se han visto frustradas al estallar

en torno a la filtración del contenido de los exámenes en esta ope también desde el principio este grupo ha tratado de salvaguardar

excelentes profesionales no solo reconocidos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma sino en el resto de españa

a todas las categorías profesionales y algunas que especialmente estaban siendo apuntadas cuando estalló el escándalo y las irregularidades

con estas irregularidades se ha puesto claramente de manifiesto que se han vulnerado los principios inherentes a un proceso selectivo los principios de igualdad mérito

y que desde luego esta ope no se ha caracterizado por la debida imparcialidad y transparencia horrexegatik esaten dugu alderdi popularrak

indudable ha sido la alarma generada por este

de la que no podía ser en absoluto ajena a este gobierno y que esto es lo que ha tratado de poner el partido popular a través de sus numerosas iniciativas y tengo que

que solicitamos explicaciones en este parlamento en relación a este escándalo solicitando la comparecencia del consejero de salud

evidente y el gobierno tenía que actuar quiero poner también de manifiesto y desde este grupo queremos poner de manifiesto

señor lehendakari ha dejado mucho que desear la gestión ha sido absolutamente deficiente tenemos que recordar que primero no se

irregularidades por parte de la propia consejera del propio consejero de la propia directora general de osakidetza la señora múgica no se quisieron reconocer esas irregularidades en su absoluta dimensión

se trató de minimizar esas irregularidades señor lehendakari se ha ido absolutamente a rebufo de los acontecimientos

se ha tomado decisiones cuando no ha quedado más remedio y tengo que recordar que ha sido el grupo popular

el primer grupo en este parlamento que puso encima de la mesa a través de una iniciativa concreta la asunción de responsabilidades políticas en este asunto y que se concretaran en la persona que en ese momento

como era la señora múgica indudablemente ha habido muchas

de la mesa todo lo que tiene que ver con las filtraciones todo lo que tiene que ver con las personas los expertos que han elaborado esos exámenes todo lo que tiene que ver con quién dio esa lista de expertos esas preguntas las ha puesto el partido popular a lo largo de todos estos meses en numerosas comparecencias

un antes y un después que fue el informe del ararteko un informe que yo creo que hay que alabar clarificador contundente con unas recomendaciones muy claras

y las investigaciones de la fiscalía que concluyeron en una denuncia que se presentó ante el juzgado

las investigaciones de la fiscalía concluyeron en las diligencias abiertas a partir de las denuncias interpuestas en los procesos selectivos bajo sospecha

correspondientes esto supuso un salto cualitativo lo dije yo lo dijo

estábamos hablando señor lehendakari de actuaciones

cuando se resolvieran en los tribunales una posible condena penal y sanción penal por lo tanto queremos

que este grupo aparte de solicitar explicaciones al consejero a la directora hemos pedido desde el primer momento

y señor lehendakari este asunto es y ha sido muy grave y es muy grave es que estamos hablando no solo del cese de la dimisión de un consejero la semana pasada porque ya no quedaba más remedio porque la situación usted sabe que era insostenible

que estaban saliendo y sobre todo a raíz del informe contundente de la fiscalía y la presentación de la denuncia correspondiente pero es que no solo ha sido la dimisión del consejero es que han sido dos ceses las personas que ostentaban la máxima responsabilidad en osakidetza el señor darpón

esto señor lehendakari no solo ya el cese de un consejero por una absoluta deficiente gestión

sino los altos cargos de osakidetza esto no ha pasado

en la historia de este gobierno señor lehendakari de su gobierno por lo tanto tendrá que hacer una reflexión profunda de cómo se han gestionado todos estos asuntos como decía la posición del partida popular

decisiva a la hora de que se adoptaran estas responsabilidades

esclarecimiento de los hechos pero como decía nuestro objetivo siempre ha sido y seguirá siendo y nos le quepa la menor duda salvar el buen nombre de osakidetza

y eliminar cualquier sombra de duda que pueda quedar sobre la gestión y la deficiente gestión que se ha hecho de la política personal y de esta ope por parte

por lo tanto hemos actuado con absoluta contundencia pero con absoluta responsabilidad en cuanto a la iniciativa que hoy debatimos la aprobación en su caso de una comisión de investigación

y entendiendo que una comisión de investigación dilucida a responsabilidades políticas que hasta la fecha se han asumido las responsabilidades o políticas que correspondían a las que no quedaba más remedio señor lehendakari para salvaguardar precisamente el buen nombre y recopilar esa credibilidad absolutamente cuestionada por esta pésima gestión que se ha hecho de todo este asunto

dado también que hay una investigación judicial en curso porque se admitido ya por parte del juzgado de instrucción correspondiente

creo que lo oportuno creo que lo que procede en estos momentos es no aprobar que se forme una comisión de investigación en este parlamento qué ha cambiado

es que han cambiado muchas cosas es que cuando debatimos la última iniciativa o propuesta mejor dicho de eh bildu en relación a la creación de una comisión de investigación solo teníamos

ahora tenemos como he señalado el cese el cuatro de enero del director de recursos humanos la dimisión del consejero un informe del ararteko

que ya se han dirimido las responsabilidades políticas que es lo que se busca con la creación de esta comisión de investigación tenemos que esperar a que la justicia actúe

decisiones pero esperemos que desde luego señor lehendakari haya aprendido haya aprendido de lo que ha sucedido porque creo que hay que la gravedad de lo que ha sucedido y obviamente entiendo que usted ha tomado decisiones porque entendía la gravedad de los hechos y esperemos y como confiamos en la justicia que todas esas cuestiones y aquellos que hayan intentado

gracias presidenta y buenos días bienvenida señora murga y toda la suerte en la gestión que

un rosario que parecía que iba a acabar pero que vemos que sigue y sigue y entiendo que quienes acusan de intereses electorales debieran de mirarse

sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación ya debatimos no hace demasiado tiempo el pasado mes de diciembre y sinceramente si en aquel momento no veíamos la necesidad de votar

votará en contra de esta iniciativa me centraré en hablar de lo que marca la propia proposición no de ley lejos de volver a analizar todo lo que parece que a algunos les interesa seguir insistiendo ayer mismo debatimos en la comisión de salud una iniciativa que ese refería al cambio de los tribunales en la repetición de los exámenes de esta ope

ni la enmienda de unos ni la enmienda de otros ni siquiera la iniciativa original porque no fuimos capaces de llegar a un acuerdo aunque existen aspectos en los que creo que estamos todos de acuerdo

y los objetivos de unos y otros son absolutamente conocidos no sé si existen intenciones reales de acordar para poder avanzar ya son muchos meses los que llevamos debatiendo este asunto nos hemos posicionado

se nos ha hecho participes de informes externos que tenían como primer objetivo

y sinceramente creo que los avances han sido escasos por ser optimistas en esta cámara y creo que todos los grupos compartimos la necesidad de trabajar porque los principios esos de los que nos hablaba la señora garrido de igualdad mérito y capacidad

principios inherentes a un proceso selectivo de acceso a la función pública por otro lado también compartimos la necesidad de trabajar en un nuevo modelo

que hay obstáculos para llegar a ese nuevo modelo y cómo se puede decir que hay partidos que miran hacia otro lado un modelo apoyado en nuevas medidas que además de garantizar que lo sucedido en la ope no vuelva a suceder mejore el modelo actual que reconocemos

que tiene ámbitos de mejora y necesidad de cubrir determinadas carencias el grupo socialista ha mantenido la misma postura desde el principio

ver dimisiones o ceses sobre la mesa aunque hoy queramos decir otra cosa

entendíamos que lo fundamental era esclarecer los hechos acontecidos poner en marcha un procedimiento mejorado tomando nota de lo que había sucedido y no politizar un proceso judicial porque quienes hoy están en determinadas responsabilidades políticas solo son coyuntura

reconocer el trabajo de los y las profesionales del sistema público de salud y dedicar todos los recursos necesarios

y puedan volver a participar en todas las garantías necesarias en los últimos meses hemos podido asistir a dos hechos importantes porque sí han pasado muchas cosas por un lado el pasado mes de febrero conocimos el hecho de que la fiscalía veía indicios de delito de revelación de secretos

y por otro lado el informe elaborado por el ararteko y que concluye con una serie de recomendaciones respecto a lo primero defendemos la independencia con la que tienen que trabajar los tribunales

y respecto al segundo por supuesto estudiarlo y analizarlo tratando con atención las recomendaciones con las que concluye entre tanto creo que no debiéramos perder de vista esos acuerdos que siempre se le dice al gobierno que deben de cumplir cuando los acordamos sede parlamentaria y creo que hubo un acuerdo fundamental e importante que alcanzamos el veintiuno de junio de dos mil dieciocho un acuerdo unánime casi en su totalidad

y pactada con los partidos del gobierno y que apoyamos siete de ocho puntos a través de una enmienda transaccional el punto uno hablaba de indignación

creo que hemos tenido ocasiones y ocasiones y ocasiones para hablar de esto el punto dos hablaba de exigencia al gobierno de esclarecimiento de los hechos a través de un análisis exhaustivo entendemos que a estas alturas no debieran existir dudas de los deseos del gobierno

el tercer punto hablaba de un informe externo de la universidad de oviedo creo recordar que antes de tener las vacaciones de verano se nos explicó

esa persona que vino de la universidad de oviedo por lo tanto punto tres cumplido punto cuatro traslado a la fiscalía de cualquier indicio de irregularidad

punto cuatro cumplido punto cinco paralización de procedimientos selectivos

punto seis hacer públicas las listas de resultados de la ope cumplido punto siete propuestas de medidas reuniones con los diferentes grupos en los que cada uno hemos podido aportar lo que hemos considerado y en eso estamos todavía es un proceso que está vigente por lo tanto

que se ve claramente la intención del gobierno y punto ocho creación en el primer trimestre del diecinueve de un grupo de trabajo para analizar el modelo de la política de personal en los procesos de selección en osakidetza

se va a denominar ponencia por lo tanto punto cumplido por tanto podríamos decir que aquellos compromisos que adquiere esta cámara casi por unanimidad

en tiempo y forma entendiendo que cada ámbito de actuación debiera dedicarse a lo que corresponde como he dicho este acuerdo fue pactado por los partidos de la oposición

ahora quieren insistir en la comisión de investigación creo que se ha llegado a un acuerdo en este pleno y creo que no se puede decir otra cosa más que que el gobierno cumple y qué quiero decir con esto que no podemos convertir a este pleno o a la comisión de salud en un tribunal político

que actúa de forma paralela a los tribunales de justicia o que pretende la fiscalía está trabajando está actuando incluso parece que ha imputado a determinadas personas que recordemos que los imputados no son acusados sino investigados la política por su parte también está actuando y creo que estamos haciéndolo bien y se han asumido responsabilidades claras

de osakidetza culminando con el máximo responsable político

diciendo que iba a dar nuestras razones para no apoyar la iniciativa de la señora ubera igual que tampoco la apoyamos en el mes de diciembre y es así como pretendo concluir mi intervención votaremos que no porque no compartimos la politización de la justicia y los intereses electorales señora ubera cuando en mayo hay elecciones

debiera estar por encima de los intereses políticos entendemos que una comisión de investigación ayudaría muy poco a la institución y perjudicaría a muchos profesionales

en su totalidad y esa enmienda apuntaba una línea de trabajo pactada por todos votaremos que no porque ayer mismo dimos el primer paso para un nuevo modelo un nuevo modelo por el que estamos trabajando todos de manos del gobierno y así podría continuar dando razones y razones porque cada vez que debatimos una iniciativa relativa a las ope de osakidetza surgen y surgen

a ser un escándalo por parte de la oposición de traer y traer esto para mantener esto en los titulares de los periódicos por tanto a partir de ahora desde el grupo socialista

ya sin excusas en el futuro modelo que es lo que queda sobre la mesa acordemos lo necesario para que esta situación no vuelva a repetirse e invirtamos nuestro tiempo en tener el mejor sistema público de salud teniendo en cuenta los profesionales de hoy y a los del futuro que

huyendo de generalidades y de acusaciones gratuitas estamos en un proceso abierto que esperamos que concluya pronto y de la mejor forma posible pero no por lo que puede revertir a los partidos políticos que estamos hoy en esta cámara sino por los y las profesionales por quienes se presentaron a esas ope y los que se presentarán a futuras
y por el buen funcionamiento de osakidetza nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

el pasado diecinueve de julio comparecía en este parlamento el señor darpón

que sindicatos y facultativos médicos habían denunciado y que el acta de elkarrekin podemos venía a corroborar

ese mismo día yo ya manifesté la necesidad de la creación de una comisión de investigación que diera a luz

era necesario crearla tras escuchar durante horas al gobierno y quedar patente que su único objetivo era el de castigar a quienes habían hecho la denuncia como así ha sido y tapar todo rápidamente queriendo hacernos creer

es decir de conceptos psicométricos no cabe duda que los exámenes son ampliamente mejorables pero de lo que se estaba hablando era algo más serio estábamos hablando de filtraciones o de delito de revelación de secretos por el funcionariado público si lo prefieren

en estos meses hemos podido conocer las recomendaciones del ararteko en relación a la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete de osakidetza y el informe de la fiscalía

lo mismo que pensábamos en julio lo pensamos ahora necesitamos una investigación que hable de filtraciones en vez de inconcreciones irregularidades o problemas sin matizar se ha perdido un tiempo valioso para todas aquellas personas

que necesitan una explicación y sobre todo una solución

que amparado en la apertura de ocho expedientes informativos en que pudo haber problemas

de anteriores responsables como son la señora múgica el señor soto o el exconsejero jon darpón en un

y así se quiere culminar esta ope y dar carpetazo

sabemos qué pasó ninguna de las medidas adoptadas

nada no estamos dando solución tampoco a los damnificados

preciosísimo para todas esas personas opositoras condenadas a repetir exámenes con las mismas oportunidades con las que lo hicieron la primera vez es decir con ninguna con los mismos tribunales con el mismo modelo corrupto

ayer mismo lo debatíamos en comisión y de nuevo no se les ha dado ninguna solución además culminando esta ope se da por bueno este modelo que no es otro

a quienes van a superar la ope y no lo digo yo lo dice la fiscal jefe necesitamos que se investiguen todas las especialidades hospitalarias porque se ha dado los mismos motivos para investigar unas especialidades y para no hacerlo en otras o para recomendar la repetición

valorar que no hace falta volver a realizar unas pruebas y sí otras véase el ejemplo de la especialidad de digestivo cuyo miembro del tribunal

hemos pedido por activa y por pasiva que la investigación en marcha llegase a sus últimas consecuencias y señalase a los responsables que procediera

y la reacción del gobierno ha sido siempre negar

de irregularidad optaron por el ataque y la negación de lo ocurrido no ha existido ningún tipo de interés por contarnos qué había ocurrido en la ope bi mila hamasei bi mila hamazazpi de osakidetza y esto ha llevado

su pésima gestión en una crisis como esta que lejos de dar solución

con ocultar las listas incluidas y se procedió abrir expedientes informativos de especialidades motivados por las evidencias que ofrecía la estadística y por otro tipo de actuaciones como la denuncia pública de dos miembros de tribunales de cardiología y angiología

sabemos que el miembro del tribunal de cardiología y lo pone en los expedientes del gobierno alertó de filtraciones en su especialidad antes de celebrarse la prueba y nadie hizo nada también sabemos que parte del tribunal de angiología señaló a una de sus miembros como la persona que filtró información de ambas pruebas que ella misma había y hoy imputada por la fiscalía y nadie hizo nada y sin embargo esto no se nos ha explicado el departamento

hace una semana consejero se escudó en la autonomía soberanía e independencia de los tribunales cuando todos ellos están intervenidos por un miembro de osakidetza no facultativo se quiso esconder

incapaz de detectar filtraciones mientras se mostraba como

se han gastado demasiados recursos y energías en intentar a todo el mundo algo que ya se sabía que existe una práctica corrupta para repartirse las plazas de especialistas hospitalarios por parte de algunos jefes de servicio una práctica normalizada y asimilada por quienes trabajan

lo que ha quedado patente es que si algo ha hecho el gobierno es proteger este modelo ope

elkarrekin podemos no cree que estas prácticas no se conociesen

y es por ello que nos han querido más que ocultar todas

que ya hemos enumerado en otras intervenciones repetición

haciendo pagar el pato a unos pocos solamente informe psicométrico que servía de coartada para que el gobierno pudiera apoyarse en algo y lo contrario

y que nos costó catorce mil novecientos noventa y nueve euros informe

porque no me imagino que se puede mejorar nada sin tener a priori un diagnóstico ni saber qué ha pasado o construir sobre un lodazal

es echar humo a esta crisis necesitamos una osakidetza

y no nos vamos aburrir de repetirlo si algo ha demostrado es que no ha querido investigar solo ha querido tapar y como más vale tarde que nunca hoy también creemos que es necesaria la creación de una comisión para que este parlamento investigue y saque a la luz todo lo que este gobierno

a dar a conocer por eso apoyaremos hoy también esta iniciativa mila esker eskerrik asko macazaga

guztiak azaltzera guztiak azaltzera no ha pasado nada a pesar de que el informe de la fiscalía dice lo que dice darpón jauna

ecosistema mutatuta un sistema corrupto

estaría formado por distintos elementos el personal

el liderazgo y la atención sanitaria que se ofrece es un sistema que tiene ocho coma dos puntos sobre diez de todos los sistemas públicos de salud en el estado ocho coma dos me quieren ustedes decir cómo un ecosistema que es tan corrupto puede tener esto

horretan hori da si desintegráramos y descompusiéramos

infraestructuras tecnología y liderazgo y es un sistema que tiene un ocho coma dos

es que este es un pueblo pequeño herri txiki bat da herri txiki bat da hau

cinco ministros reprobados han tenido ustedes y ninguno dimitió

aquí aquí fíjense las responsabilidades políticas que

horretarako erabiltzen dozue la política del escándalo la política del escándalo manuel castells la definió estupendamente la definió estupendamente decía

los escándalos él se refería son luchas por el poder simbólico

en la era de la información el poder simbólico es la principal fuente de información y en eso decía una vez que se crea el mercado para esa información

si no existe suficiente material pues bueno hacemos insinuaciones

insistimos ocultamos la realidad y se sigue avanzando por supuesto todo depende de la ética individual de cada una de nosotras de cada uno de nosotros y de quienes lo cogen o mueven medios de comunicación etcétera y afirmaba también en el estadio superior a la política de los escándalos es la investigación parlamentaria donde algunos miembros de esas comisiones parlamentarias eta gu ere egon gara

da lotsa barik ekitea eta esaten dabe donde algunos de esas comisiones

debidamente hacen medidas filtraciones para que se puedan sacar así son héroes para los medios de comunicación con tal de conseguir el objetivo eta amaitzen eban denbora amaitu dodalako

es que todos los actores políticos que la practican quedan atrapados en la misma trama y el cazador de hoy el cazador de hoy
es la presa de mañana eskerrik asko

operación osakidetza ope y el rosario va a continuar

por el buen nombre de osakidetza ikerketa batzordea atzera

baina bueno y a eso se le llama contundencia actuar con contundencia en el buen nombre de osakidetza en fin baina

eso es lo que proponíamos con nuestra propuesta luz y taquígrafos luz y taquígrafos son las irregularidades de la ope de osakidetza transparencia

a qué tienen miedo ez jarri isiltasunaren legea

gracias señora presidenta lo esperado señora gorospe bastante lamentable su intervención

porque el tema no tiene defensa posible es que esto no había sucedido nunca es que esto no había sucedido nunca en euskadi

ustedes y les ha sucedido con el lehendakari el señor urkullu

y no se tienen que aclarar y no se tienen que asumir responsabilidades pero usted cree en la democracia y cree en el estado de derecho mire si tanto creía el consejero en su gestión y en que ha salvado

asistimos a dos declaraciones contradictorias primero dijo el señor consejero

se iba luego dijo que no se iba por qué no han aguantado ustedes por qué no han aguantado el debate hoy aquí de una reprobación si tanto confiaban en la gestión del consejero de salud

que aceptar la dimisión del consejero de salud el señor darpón

de la señora múgica y del señor soto para parar el golpe de este escándalo señora gorospe mire es que la gravedad de estos hechos

en que ha tenido que dimitir el máximo responsable de la sanidad pública vasca y los dos máximos responsables del diseño y la gestión de esta ope y de la gestión de todas las irregularidades de este

hombre me habla usted de escrúpulos cuando el partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados y en madrid no ha tenido escrúpulos en reprobar ministros

una semana aprobando los presupuestos y la siguiente semana con sus cinco votos decisivos echar a un gobierno me habla de escrúpulos el partido nacionalista vasco pero el partido nacionalista vasco qué se cree aquí pero osakidetza es del partido nacionalista vasco mire

principalmente a todos los buenos profesionales que trabajan en osakidetza

y quienes desde luego han empañado el buen nombre de osakidetza

que han hecho una gestión absolutamente deficiente de todo este escándalo de irregularidades que se han detectado

lo he dicho en mi primera intervención aparte de las exigencias que desde luego este grupo ha puesto encima de la mesa de asunción de responsabilidades políticas y del esclarecimiento total de los hechos además los hechos se van a esclarecer señora gorospe

porque todos aquellos que han querido empañar el buen nombre de osakidetza

y ahí como ya se han asumido las responsabilidades políticas que corresponden

ahí se van a esclarecer los hechos y se van a dilucidar las responsabilidades penales que correspondan ese será el momento sobre todo en el que quede salvado

porque mire el informe de la fiscalía que concluye en que se interpone la denuncia correspondiente ante el juzgado competente

y eso supuso un punto de inflexión para este gobierno y para el lehendakari que junto con el consejero adoptan la decisión me habla de electoralismo pero si ustedes han tomado esta decisión

que han hecho ustedes de tener que hacer dimitir a un consejero

y porque vienen dos procesos electorales no serán ustedes que son los que ya han jugado con cálculo electoral mire le hablaba

y que ha sido admitida a trámite ese informe supuso un salto cualitativo esta denuncia supuso un salto cualitativo pero no solo

es que no son irregularidades administrativas es que estamos hablando de actuaciones presuntamente delictivas y había una responsabilidad política claro

que diseñaron y gestionaron esta ope y obviamente del máximo responsable

este informe supuso también un salto cualitativo porque ha quedado en evidencia que el gobierno con el consejero

y como nosotros confiamos en la justicia todo esto afortunadamente

y aquel que no ha dicho la verdad y si se ha mentido a este parlamento y si se ha jugado con el parlamento desde luego va a quedar descubierto en los tribunales y ese será el momento

de los hechos y la asunción de las responsabilidades penales que correspondan

el resto se lo voy a dejar a la señora gorospe sinceramente usted ha hecho hoy lo que lleva haciendo desde el momento en que salta el escándalo de las ope

que sinceramente no se entiende lo que lleva haciendo usted porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que vota cosa que hoy me alegro pero sinceramente entiendo que la señora gorospe ya le dará todos los argumentos que tenga que darles luz y taquígrafos nos decía la señora ubera

hemos sido informados todos de forma pública y privada sí

sí creo hemos tenido todos la oportunidad y el acceso a las actas expedientes y documentación requerida en lo que tiene que ver con las ope sí o no creo que usted fue una de las personas que acudió de las primeras a poder leerlas por lo tanto ha podido hacerlo se ha llevado el tema a la justicia porque se entendía que podía haber

se ha llevado verdad bien estamos participando todos en aquel modelo que ustedes como oposición plantearon a los partidos del gobierno sí o no cómo se puede decir que estamos intentando obstaculizar y no trabajar en lo que tiene que haber con el esclarecimiento de los casos la señora macazaga nos hablaba antes de un modelo corrupto y mafioso así gratuitamente lo sueltan aquí porque aquí todo vale la libertad de expresión que nos da la tribuna todo vale

unos son quienes escuchan quienes trabajan quienes aportan y quienes velan por los intereses de los ciudadanos vascos y otros somos los que obstaculizamos permitimos corruptelas y e intentamos ocultar todo lo que tiene que ver con el tema de las ope

me parece profundamente injusto porque esa enmienda de la que ustedes no quieren hablar y que acordamos todos en junio ustedes saben el trabajo que nos llevó a todos la redacción para poder acordar pero lo que no se puede señora ubera es al final intentar destruir los puentes que creamos

a todos y que entre todos teníamos que poner en medio las herramientas déjeme hablar que yo le he escuchado las herramientas y las medidas para que esto no volviera a suceder y llega usted aquí casi diez meses después y empieza su intervención de la réplica diciendo y el rosario continuará claro que continuará

de rentabilidad de intereses particulares económicos y clientelares de que queremos pasar por encima de todo y que expandimos la estrategia del chipirón que nos ha dicho catorce veces calculo electoral de quién

de quién no no de quién porque yo entiendo y no llevo tantos años en política como muchos de los responsables del partido nacionalista vasco

por intereses electorales entiendo no sé en mi humilde opinión

digo yo no sé tienen bastante más experiencia que yo llevan gobernando muchísimos años

y no me parece justo algunas de las afirmaciones que ustedes están diciendo y luego otra perla que nos suelta es ustedes a quienes apoyan el sistema

es que ustedes son sistema cuando les conviene ustedes qué pasa qué han aparecido por aquí en una

usted es tan parte del sistema como yo con una diferencia que ustedes nunca han participado de la construcción de lo que tiene que ver con este país porque siempre han estado enfrente

porque parece que solo ustedes se reúnen con profesionales y con personas afectadas por las ope y yo no digo que no porque a usted le reconozco una cosa verdaderamente trabajo

para aportar para intentar buscar soluciones y sobre todo para cuando se llega a un acuerdo cumplirlo

toda la enmienda transaccional que usted y yo y el resto de portavoces pactamos aquel día en junio y me parece que no se puede uno abstraer del sistema cuando le conviene y ser protagonista del sistema

señora ubera porque usted y yo formamos parte del mismo sistema del mismo y no se puede decir las barbaridades que se están diciendo

de una institución absolutamente valorada y referencia para muchas comunidades autónomas reconozco que hay un ámbito de mejora sí

el tema de las oposiciones ha resultado un problema para el gobierno sí

a hablar de este tema pero lo que no se puede decir es que lo intentamos solucionar a través de pataletas cómo pataletas

y haber votado en el no siempre e intentar no acordar nada con los partidos de la oposición usted era la protagonista y es verdad en la necesidad de trabajar en el futuro modelo y en eso es en lo que estamos trabajando pero no se puede acusar en este caso a los partidos del gobierno ni de obstaculizar

y lejos de criticar lo que estamos cumpliendo debiéramos todos trabajar a la vez para que esto no vuelva a suceder y lo de los intereses electorales creo que se lo debieran de mirar

y cada vez más cerca de las elecciones nada más y muchas gracias eskerrik asko

la fiscalía requiere a osakidetza un montón de documentación como por ello interesa requerir a osakidetza

con su centro de referencia y miembros del tribunal de las especialidades mencionadas en el apartado de hechos con su cargo y centro de referencia nosotros también lo pedimos nunca se nos ha dado

con las declaraciones realizadas y la totalidad de las actas que hubieran

y mucho más quiero decir que fiscalía no tiene toda la documentación

público vasco de salud en su totalidad yo creo que hoy estábamos hablando del fraude del acceso al funcionariado en osakidetza y es verdad que

y será la justicia quien dirima responsabilidades penales si las hubiese

buscamos saber qué pasó para dar soluciones y desde luego depurar toda responsabilidad política si es que se pudiera dar se empeñan en decir que el gobierno tiene el compromiso de investigar hasta el final y el problema es que no lo ejecuta lo único que pone

es que no se quiere que la ciudadanía se entere de nada y las filtraciones se queden como una mera especulación y pasen a la historia como tal cuando ya todos y todas sabemos que las filtraciones son una realidad y así lo constata la caída de la señora múgica el señor soto

porque existe un problema y no son capaces de asumir que se vulneró un derecho fundamental en estas ope se vulneró la igualdad de oportunidades y el gobierno

que pensemos que fue debido a un modelo de corrección erróneo y lo mezclan todo con los demás

y están ahí intentando dar nombre incluso a una operación pnv

pero yo no creo que estemos en eso yo al menos estoy a intentar dar solución a una gente

se aceptó un modelo corrupto evidentemente que permite elegir

antes incluso de diseñar el propio examen el departamento de salud lo conocía

pero no solo eso cuando le dimos la oportunidad de denunciar este modelo solo quisieron negar

que no trascendiera más de la cuenta mencionando incluso palabras comodín como casos aislados efectivamente

diez meses después de estallar la crisis de las ope el gobierno

se ha investigado unas categorías pero en detrimento de otras que cumplen los mismos parámetros que el departamento de salud determinó como válidas para investigar y no lo décimos nosotros esta arbitrariedad la expresa el ararteko en sus recomendaciones y la fiscalía jefe en su informe y esto nos lleva

con ciento veinte opositores para cincuenta y cinco plazas en las que aprueban cincuenta y seis con notas máximas de cien en el hospital del alto deba el que hicimos el acta notarial elkarrekin podemos el servicio lo forman

son fijas y dos de ellas miembros del tribunal las otras cinco personas son interinas y obtienen la plaza con nota superior a noventa elkarrekin podemos en una segunda acta de manifestaciones como he dicho y el informe de la universidad de oviedo señala que la distribución de las puntuaciones no se ajusta a una distribución normal

pero sin embargo en esta se decide que no se repite y todo queda en una bronca al tribunal la ope de urología con catorce plazas y catorce opositores aprobados o la de digestivo que lo he mencionado

estamos hablando de seis hay muchas más sin investigar nos vamos a quedar con la duda yo no estoy dispuesta quiero que se investigue por eso apoyo esta comisión de investigación quiero saber qué ha ocurrido

ni ahora solo se puede entender de dos formas no querer saber o que ya saben y no necesitan saber

que yo y conocen lo ocurrido para lo cual no necesitan ningún tipo de investigación termino como lo hice el doce de diciembre el parlamento debe tener la capacidad

ha querido ocultar sacar sus propias conclusiones depurar responsabilidades y también tener la oportunidad de colaborar con la justicia una vez

andrea la fiscalía ha pedido más información en osakidetza el gobierno le ha enviado la información que considera oportuna la fiscalía pedirá más se pedirá más información y se seguirá enviando

hombre tres personas tres funcionarios tres funcionarios insisto sin ninguna responsabilidad política investigadas cuando estamos hablando de un procedimiento

ochenta y seis tribunales tres mil trescientos treinta y cinco plazas y más de mil trescientos personas que conforman los tribunales pues usted me dirá de qué estamos hablando

mover esto a ver podemos nació su hábitat natural son las aguas revueltas en el ámbito institucional nacieron de aguas revueltas y es ese el hábitat que necesitan ustedes para pervivir a falta de otro proyecto

claro que continuará no tengo ninguna duda señora rojo claro que continuará eso lo tienen absolutamente marcado y esto continuará

a corto plazo esto es una cuestión electoral estructural es una operación de derribo la cuestión es que en un pueblo pequeño desprestigiar al que tiene una solvencia y al que tiene un prestigio por

de gestión pues es mucho más complicado non dago isiltasuna

hubiéramos aguantado encantados políticamente hubiéramos aguantado encantados

y ahí fue múgica y fue soto quienes decidieron a pesar del riesgo de desgaste

quienes decidieron apartarse a un lado para proteger

para que todo esto pudiera rebajarse para que semana a semana no hubiera iniciativas que pidieran su dimisión continuamente nosotros hubiéramos aguantado perfectamente y además le digo más encantados nos hubiera encantado poder aguantar y estar apoyándoles

que los cínicos no valen para el periodismo la realidad es que el periodismo está lleno

el cinismo y los cínicos tampoco valen para la política

impúdica deshonesta que nos aleja mucho de lo que es nuestra función de lo que deberíamos hacer creo que

entiendo que ustedes no tengan que rendirle ningún homenaje pero desde luego nosotros sí tenemos que rendir homenaje a quien ha hecho un esfuerzo personal hace poco vi una

oscarizada y hubo una secuencia que me gustó mucho estaban en una celda el doctor que no era médico porque como estamos hablando de temas médicos sino un excelente y un brillante música y lip su chófer un italiano que había ido a américa y el doctor

color y además gay en una américa racista y homófoba y ante un ataque

y él el doctor le decía pero qué clase de nuevo idiota eres por qué atacas con violencia así no ves lo que pasa cómo están ellos

de café a mí lo que me dijeron seguía el doctor es que solo ganarás cuando mantengas la dignidad porque la dignidad

pagando el pato por algo que no he hecho eskerrik asko eskerrik asko gorospe

llanos anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko no sé quién se ha dejado aquí las gafas

gracias

mucho hemos debatido en este pleno sobre vivienda sobre la responsabilidad de los poderes públicos de hacer efectivo ese derecho constitucionalmente

se aprobó una ley que aunque ya dije en su momento que era necesaria esa ley de vivienda y nosotros lo habíamos demandado en muchas ocasiones no bastaba cualquier ley y de hecho muchos de los artículos de esa ley de vivienda siguen sin desarrollarse

que la misma se venía a trasladar lo que era una responsabilidad de los poderes públicos el garantizar la efectividad del derecho a la vivienda a través de un parque público suficiente

al que se le podía llegar a confiscar su vivienda imponiéndole por ejemplo el alquiler forzoso vulnerando así su derecho a la propiedad privada no obstante

ilegal de viviendas la ocupación de viviendas es un asunto que preocupa

porque afecta gravemente a la convivencia vecinal y porque pone en grave peligro la seguridad de las personas y los bienes y es que junto a la ocupación lo que ya supone como décimos una vulneración del derecho a la propiedad vemos también otra serie de cuestiones anexas cuestiones que también suceden en euskadi

lo que provoca riesgos no solo a las familias ocupantes sino a todo el entorno tenemos ejemplos de ello

con tres muertos y veintinueve heridos debido a la manipulación del cuadro eléctrico de una vivienda

o más cercanos cuando este verano por ejemplo en aretxabaleta en pisos de la sociedad ensanche veintiuno de vitoria donde

a los okupas por parte del ayuntamiento según pone de manifiesto etxebizitza o sea es decir que no solamente desde el partido popular hablamos de la ocupación también desde aquí

de madrid según datos de la delegación del gobierno en septiembre del año pasado había ocupadas ilegalmente

viviendas en el año dos mil diecisiete las actuaciones policiales relacionadas con la ocupación de viviendas habían crecido un seis por ciento con relación al año anterior es cierto que madrid y cataluña son las comunidades con más número de viviendas ocupadas ilegalmente

ajenos a este fenómeno de la ocupación y es un fenómeno que está empezando a preocupar y preocupa especialmente como decía aquí en vitoria

del casco histórico y en muchas ocasiones las viviendas ocupadas son propiedad de las instituciones públicas y como decía tenemos casos palmarios

un barrio que en el plan que se llevó a cabo en la anterior legislatura se desalojó para su derribo porque eran

eran viviendas que presentaban riesgos estructurales y así lo declaró un informe elaborado por el propio ayuntamiento informe que curiosamente

no ha llegado a tener consecuencias informe que curiosamente se ha guardado en un cajón y que se ha preferido mirar para otro lado y lo mismo pasa en vitoria

es que en vitoria hay hasta una oficina de la ocupación hay carteles

que informan de dónde está esa oficina que dicen qué pasos hay que seguir para ocupar ilegalmente una vivienda y eso está

de consentir semejante cosa en febrero conocíamos también por ejemplo que una joven de bilbao no había podido acceder a su piso de alquiler social

quien estaba necesitada quien necesitaba una vivienda y por ello se le adjudicó una vivienda de alquiler social no pudo acceder a la misma porque cuando fue a acceder en ejercicio de su derecho reconocido por una institución tenía dentro el parque público de alquiler no es suficiente

las autoridades públicas deben actuar con firmeza y que no es suficiente claro y tienen que acudir a instrumentos como bizigune o como asap para poder tener más viviendas públicas

hay que actuar con firmeza como decía el propio etxebizitza pone de manifiesto que para las administraciones públicas las ocupaciones de su vivienda

costes de gestión pero también de credibilidad política y situaciones de crisis permanente al no poder atender las exigentes demandas de las personas iguales con necesidades

está cambiando ya no solamente nos encontramos con familias sin recursos hay personas que ocupan para otros fines totalmente distintos

que han visto un nicho de negocio rápido fácil y rentable en la ocupación ilegal de viviendas así rastrean las ciudades en busca de viviendas vacías comprueban los carteles de ventanas anuncios de prensa etcétera así se crea un nuevo mercado un mercado negro en el que

adjudican a terceros por un precio que evidentemente no es un precio de mercado creando así una segunda generación de okupas que después de pagar el alquiler

ocupan la vivienda o la subalquilan a su vez creando un círculo vicioso tremendo otras mafias persiguen al ocupar las viviendas fines relacionados con sus ámbitos habituales de negocio y los utilizan como

actividades ilegales por ello a pesar de que ha habido una modificación

sigue creciendo porque como digo las mafias han encontrado un nicho de negocio que no están dispuestos a perder porque como digo

para actividades delictivas así en bilbao la vieja es el lugar que según el ayuntamiento en el que iban a convertir

rejas en sus viviendas porque las viviendas de al lado están siendo ocupadas para delitos de tráfico de drogas

nada ante ello es verdad como decía que la nueva ley cinco barra dos mil dieciocho establece mecanismos para agilizar el proceso esta norma protege a los particulares y a las administraciones públicas para recuperar

finalidad que no es otra que facilitar a las personas que lo necesitan una vivienda es decir a aquellas que están en las listas oficiales de demandante con criterios de preferencia y criterios de legalidad esa ley sin embargo no incluye a las entidades financieras ni a fondos de inversión y promotores en estas viviendas las mafias siguen teniendo un nicho y siguen estas viviendas dando problemas de convivencia a los vecinos por ello el partido popular propuso una proposición de ley que iba a proponer en el congreso de los diputados en el que se contenían medidas pioneras antiokupas qué medidas

en esa proposición se define por primera vez de forma clara qué es la ocupación ilegal el tener ya esa definición

unas consecuencias beneficiosas a la hora de aplicar el resto de legislación

pago ni renta ni tolerancia del propietario o poseedor real

no puede tener la consideración de morada o domicilio de manera que los

en un piso pagando su alquiler también la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas en un plazo de doce horas sin necesidad de esperar

refuerza medidas legales que ya existen refuerza el delito de usurpación elevando las penas impuestas al mismo agiliza el proceso penal para juzgar este tipo

se amplía la reforma de los procesos civiles aprobada como decía en junio dos mil dieciocho para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer

a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente esta medida contribuye además a mejorar la convivencia en las comunidades de propietarios

motivo como decía por el cual son elegidas para la ocupación ilegal porque su desalojo es mucho más dificultoso que cuando los propietarios

un particular también refuerza los medios al alcance de la comunidad de propietarios en aras a la convivencia vecinal lo que permite prevenir la ocupación con medidas como tapiar la puerta de entrada y para una mayor seguridad y poder combatir conductas incívicas al poder acudir a la autoridad cuando los ocupantes ilegales realizan actividades prohibidas molestas incívicas e insalubres modificando la ley de propiedad horizontal para ello la nueva norma también consideraría nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona que

ese empadronamiento no daría derechos y podría anularse de oficio a instancia del propietario o poseedor legítimo modificando para ello la ley de bases de régimen local

no es para regular ni los desahucios hipotecarios ni los arrendaticios no estamos o no queremos regular con esta ley el denominado precario es decir cuando una persona estaba alquilada o tenía un título jurídico para vivir en un piso y este se acaba y permanece en el lugar porque en este caso el procedimiento a aplicar

estamos regulando los desahucios hipotecarios lo que se pretende es luchar contra la ocupación ilegal contra lo que es delito se mire por donde se mire queremos que se proteja el derecho a la propiedad privada sin olvidar la función social y la seguridad en la convivencia

contra una forma de delincuencia contra ilegalidades de la ocupación

y con la protección a familias que están en situación de emergencia social porque para conseguir esa protección el partido popular ya puso en marcha medidas nada más acceder al gobierno ya desde el año dos mil doce se pusieron en marcha reformas legales de apoyo y amparo a las familias en situación vulnerable o a las familias más entre las primeras medidas que se aprobó quiero recordar con carácter excepcional y temporal la suspensión de lanzamiento sobre viviendas

vulnerables a través del real decreto ley veintisiete barra dos mil doce real decreto ley que fue aprobado y tramitado como proyecto

uno barra dos mil trece de medidas para reforzar la protección

posteriormente el real decreto seis barra dos mil doce también

para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual por último se aprobó el real decreto ley cinco barra dos mil diecisiete que modifica el anterior seis barra dos mil doce

y además ha habido a lo largo de los gobiernos del partido popular distintos planes de vivienda

por lo tanto insistimos no queremos que se confunda lo que es un delito repito la ocupación ilegal de una vivienda con la protección a aquellos en situación de

acceder a una vivienda esta ley que cuyo apoyo hoy proponemos traería consigo un refuerzo del marco jurídico actual implantando nuevas medidas

y que la policía pueda desalojar en doce horas y traería consigo como también he dicho la modificación de seis leyes la ley orgánica del código penal

y la ley reguladora de bases de régimen local todas las personas somos portadores de derechos y obligaciones y todas sujetas a códigos legales que debemos respetar tenemos en euskadi muchas personas que demandan una vivienda todos los días tenemos miles de demandantes inscritos en etxebide que necesitan una vivienda en alquiler pelear contra la ocupación ilegal

además de para garantizar el respeto a la ley que en democracia es imprescindible para garantizar el acceso legal a una vivienda de quien

no hay nada más que pedir a los grupos del congreso de los diputados que voten a favor de una proposición de ley

permanente en todo caso el voto de unidos podemos sería que no y no iba a empezar así pero usted ha relatado no sé un montón de decretos y de medidas que había tomado el gobierno del partido popular para evitar los desahucios dos mil dieciocho record con todas esas medidas del partido popular joder funcionó de la leche todas esas medidas

no cabe duda que la vivienda es un problema y lo hemos traído a este parlamento es uno de los principales problemas de los vascos y de las vascas de la juventud es un problema que enquista la precariedad

de la vivienda la precariedad que cercena el derecho a tener proyectos de vida autónomos eso es el problema de la vivienda por si no lo sabe vamos a sacar algunos datos sesenta y seis mil demandantes de vivienda protegida

personas que manifiestan necesitar cambiar de vivienda la edad media para emanciparse en euskadi por encima de los treinta años cuando la media en europa es de veintiséis más de veinte mil viviendas vacías gestionables

se movilicen esas viviendas la renta media del alquiler en euskadi ha superado ya los mil euros de eso usted tampoco dice nada más de mil euros quién puede pagar eso

ni una palabra del partido popular sobre eso el número de desalojos en euskadi en el segundo trimestre

aumentó el ocho por ciento de eso tampoco dice nada el partido popular

a los desahucios ustedes vienen aquí a desviar la centralidad del problema

no hablan ni dicen nada sobre que se esté echando a gente de sus casas

porque no puede porque tienen trabajos precarios o que no pueden emanciparse jóvenes de nuestro

para abordar de forma demagógica populista una realidad que el gobierno vasco no sé usted ha citado etxebizitza no sé a qué organismo se refería pero mira el observatorio vasco de vivienda dieciocho de febrero de dos mil diecinueve

ocupaciones ha venido siendo sencillamente irrelevante

pero en españa puede ser una realidad pero en estos momentos aquí el gobierno vasco dice que es irrelevante

podemos y en el estado español el setenta y cinco por ciento de las viviendas ocupadas ilegalmente vamos a decirlo así son ocupadas por personas no conflictivas y derivadas de casos

para ver por qué esa gente está ocupando esas viviendas y ese setenta y cinco por ciento es por necesidad que no es por vicio

situación cómo no de nuevo el partido popular criminalizando a la pobreza que es lo que usted

criminalizar la pobreza eso es lo que están haciendo ustedes de nuevo y además una iniciativa

dudas legales porque es una iniciativa que yo creo que es inconstitucional

de la constitución española el domicilio es inviolable ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial

vaya allí y desaloje en veinticuatro horas un supuesto una supuesta ocupación lo que hacen es propaganda eso es lo que están haciendo propaganda porque tienen miedo a ese competidor por la extrema derecha que les ha salido porque además en la última reforma de la lec que usted creo que

a los jueces que en cinco días se pueda ordenar ese desalojo esa es la diferencia entre un estado de derecho

determinando igual le venía bien hacer caso a las palabras del señor sémper la semana pasada respecto a la policía y se olvidan también de la función social de la vivienda el tribunal constitucional ha dicho reiteradamente que este derecho está delimitado

de la vivienda también artículo de la constitución española artículo treinta y tres la función social de estos derechos delimitará su contenido y además también

pero eso está artículo cuarenta y siete regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación eso también está en la constitución y no han dicho nada ustedes y luego

los datos de lo que hay la ley protege a los propietarios particulares de este tipo de situaciones lo que no protege y es lo que a ustedes les duele y por eso están trayendo esto es a los fondos buitres a los bancos y a las inmobiliarias a esos sí que no

puede usted leer el acta de sesiones del congreso de los diputados ya se debatió

de los fondos de inversión y de los fondos buitres esos son los verdaderos okupas esos son los verdaderos okupas los fondos buitres que se están quedando con la viviendas de todos y de todas

ana botella militante de su partido militante de su partido que vendió miles de viviendas públicas

que aumentaron casi el cincuenta por ciento el alquiler sorpresa también la política de vivienda del partido popular y sabes usted que mañana hay un desalojo en una vpo en donosti

vivienda propiedad de ese fondo

no ha dicho nada de eso el partido popular no ha dicho nada de eso van a presentar alguna iniciativa con ese desahucio mañana en suelo público señores del gobierno señor arriola señor erkoreka señores del pnv señores del partido socialista van a impedir el desahucio de mañana un desahucio

yo creo que ese es lo central de hoy que mañana no haya un desalojo en euskadi y además en donosti una ciudad que

sin desahucios por eso desde elkarrekin podemos seguimos hicimos la enmienda tampoco nos ha llamado el partido popular tampoco ha habido un interés en acordar por eso estoy en un acto

que aquí lo único que hay que hacer es garantizar el derecho subjetivo a la vivienda eso es lo que hay que hacer y lo que este gobierno no está realizando

y también modificar esa ley de arrendamientos urbanos que no ha sido modificada todo lo que tenía que ser modificada para regular los precios del alquiler ese es el quid de la cuestión

lo urgente que afecta a la sociedad vasca la garantía

digna para todos y para todas que a nadie se le eche de su casa que todo el mundo tenga derecho a un techo digno que los alquileres sean

desde elkarrekin podemos desde unidos podemos en el congreso también para que esa ley de arrendamientos urbanos limite por fin los precios del alquiler que se le ponga techo a esa escalada de

país y no vamos a permitir ni la más mínima triquiñuela ni la más mínima acción populista que desvíe la atención ni el más mínimo juego electoralista

en el día de hoy porque estamos en este tema de la vivienda ante uno de los mayores problemas que afectan a la sociedad vasca y por eso mismo exigimos que se actúe en consecuencia con la seriedad y rigor que el tema se merece y para acabar ya que el día

como canta sa soziedad alkoholika hace mucho que

tenido la desgracia de no verles hace mucho sa nos hacía corear que todo esto

esto huele muy mal con la de pisos vacíos que hay en la ciudad eskerrik asko

andrea no pensaba iniciar así mi intervención pero voy a comenzar realizándole dos peticiones al señor martínez la primera

y segundo cuando habla usted de demagogia de populismo

de electoralismo le recomendaría que antes de decirlo repasara sus intervenciones para no caer en los errores que usted ha caído hoy y hacer precisamente lo que usted denunciaba

que ha dicho usted al inicio de su intervención ha dicho la vivienda es un problema mire donde ustedes ven un problema nosotros vemos un derecho para nosotros la vivienda no es un problema es un derecho que debemos garantizar por eso nosotros entre otras cosas vamos a votar en contra de la proposición que ha presentado el partido popular tal y como también hicimos

de ley que en su momento registró este mismo partido en el congreso de los diputados la última modificación al respecto de lo que presentó hace unos meses el partido popular en el congreso de los diputados vino

nosotros en aquella ocasión también votamos en contra después de haber presentado una batería importante de enmiendas que por supuesto fueron rechazadas por el propio

medidas procesales no hay ningún tipo de solución no hay ningún tipo de objeto que nos lleve a atajar a resolver un problema

el señor martínez en el dos mil dieciséis con un repunte

como barcelona gobernada no precisamente ni por el partido popular ni por el partido socialista en el año dos mil dieciséis los socialistas por tanto

esta modificación al igual que como he dicho rechazamos la proposición de ley que presentó el partido popular en el congreso de los diputados por qué porque nos negamos a criminalizar

que no tiene en estos momentos alternativas habitacionales para acceder a una vivienda la solución no es establecer medidas penales medidas civiles es proteger el derecho a la vivienda es garantizar la intervención de los servicios sociales en todas aquellas situaciones en las que se detecte riesgo o existencia de vulnerabilidad social

ese debe de ser el empeño de todo gobierno para atajar problema debe combatirse la ocupación por supuesto que sí debe de combatirse la ocupación debe combatirse la ocupación

a las mafias que están haciendo un uso indebido y se están aprovechando de las personas que menos recursos por supuesto que hay que atajar a la ocupación pero ojo el objetivo del partido popular parece que no es

la ocupación única y exclusivamente en el caso de las mafias parece ser que estas propuestas que el partido popular está trayendo solo tienen un objeto crear una sensación un clima de inseguridad ciudadana que a todas luces en estos momentos no existe

en el tono en el nivel que ustedes nos están trayendo aquí por tanto las propuestas solo traen un punto de vista penal un punto de vista

de sociedad es un modelo en muchos casos no social sino policial por tanto nosotros

apostamos por este tipo de medidas la finalidad última de toda proposición legal para el grupo parlamentario socialista para el partido socialista obrero español toda finalidad última de proposiciones legales relativas

que garantizar una vivienda digna para todos y para todas hay que definir por tanto cuál es el objeto a proteger bienes o personas por supuesto primero las personas primero

que luego no se deban de proteger los bienes pero ante todo y sobre todo a los primeros que debemos de proteger son a las personas evitando la vulnerabilidad

por tanto estamos ante una proposición de ley que usted como persona disciplinada que le tengo ha traído a esta cámara atendiendo

pero que efectivamente tiene un serio déficit en cuanto a la constitucionalidad porque hay cinco puntos cinco cuestiones que atentan directamente contra lo que establece nuestra constitución primero limita la inviolabilidad del domicilio al eliminar la protección

ante la actuación de la autoridad pública o sus agentes cierro comillas es decir

segundo porque establece plazos de veinticuatro horas para dicho desalojo no judicial del inmueble si el ocupante no acredita el título jurídico por el que está en el inmueble pero no especifica quién dirime sobre la validez de este título jurídico ni mucho menos dice que sea la autoridad tercero porque se establece un desalojo preventivo no judicial y el desalojado es luego quien tiene que acudir al juez si considera injusta la medida algo

cuarto porque las comunidades de propietarios podrán acudir a la policía sin ir a la vía judicial para promover

no se especifica en ningún caso que ninguna autoridad judicial valore que concurren esas conductas o actividades prohibidas y quinto porque establece

de un ocupante de oficio por el ayuntamiento o la instancia del propietario sin añadir más requisitos como una resolución judicial que establezca que sí ha habido una ocupación por tanto estamos ante una proposición de ley que es absolutamente inconstitucional el setenta y cinco por ciento de la ocupación

no conflictiva que tiene una necesidad extrema de una vivienda

ustedes mandan a la policía nosotros ponemos instrumentos al servicio de esas personas para resolver su situación de

o de pobreza extrema gracias al partido popular la mayoría de las ocupaciones se resuelven por la vía rápida por la vía civil sin ningún tipo de solución

de alternativa habitacional a la calle sin mediaciones se manda a la policía y ustedes salen de aquí eso no es proteger a las personas ese es su modelo justamente

al nuestro señora llanos y en euskadi pues sí pues se está trabajando y además se está trabajando bien

desde el gobierno que ponen de manifiesto nuestro compromiso con las personas primero redactando un decreto que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda con un sistema legal con un sistema público con un sistema transparente con instrumentos con entidades como etxebide como alokabide

con convenios con los ayuntamientos para poner en el mercado

viviendas que pertenecen a ayuntamientos a entidades diversas para aumentar el parque público destinado a este fin con protocolos de intervención a través del convenio que se ha firmado entre eudel el tribunal superior de justicia del país vasco

y el gobierno vasco en fin yo creo que en euskadi el porcentaje

ilegal de viviendas no es precisamente el de otras comunidades autónomas el de otros lugares creo que aquí afortunadamente estamos viviendo una situación infinitamente diferente gracias entre otras cosas a que este gobierno está comprometido con sus ciudadanas

a situaciones de riesgo de vulneración y de pobreza por tanto frente a las mafias ninguna duda la contundencia del estado de derecho frente a los problemas sociales a los problemas habitacionales a los problemas pueda tener porque no tenga recursos sin duda soluciones políticas que acaben con la desigualdad con la exclusión social y designándoles

que es una vivienda digna eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

empezando por el final y para que no se me olvide señor andueza estando

en el tono y en la orientación de su discurso no estaría de más recordar también que la ley de vivienda vasca se aprobó en el año dos mil quince y tenemos

no se han desarrollado también me remito a las palabras del propio viceconsejero

en un artículo de opinión reciente en el que decía que tenemos la posibilidad de movilizar

a través de la ley con lo cual yo no voy a decir que no está trabajando pero evidentemente se está trabajando

con menos prisa o menor urgencia de la que entiendo se debería

vincula usted las cuestiones de la ocupación con las cuestiones de la pobreza y la

pues efectivamente démonos prisa en desarrollar todo eso

dicho esto y voy a la proposición original yo creo que hoy ustedes no han venido a pedir el apoyo de ninguno tipo a pesar de que los dos puntos de su proposición hablan de dar apoyo a una ley que ustedes han presentado

una propuesta de ley estamos hablando de las cortes disueltas en este foro

unas competencias en materia de vivienda que las está desarrollando además es muy gracioso que ustedes hayan presentado esto aquí y en el ayuntamiento de gasteiz

de ayuntamientos del resto de capitales de la comunidad autónoma entonces lo que está claro es que ustedes lo que vienen hoy es a marcar una posición política a embarrar

su propuesta ustedes buscan reforzar una campaña electoral que ya tienen muy marcada

intentan enfrentar a los últimos con los penúltimos y creo que es hora de decirles cuatro cosas además

vamos a votar por supuesto con un rotundo no a lo que ustedes proponen permítame decirle que su propuesta de hoy igual que la ley que han propuesto en madrid es infame es infame porque tanto hoy aquí

ustedes hablan con una tecnología bélica directamente bélica

ustedes hablan de mafia ustedes hablan de alarma y ustedes vinculan

con actividades delictivas y en esa vinculación y en ese escenario de guerra que ustedes están intentando presentarnos lo que hacen es pretender criminalizar encarcelar porque también lo proponen sacar del padrón a miles de personas que se encuentran

expulsadas muchas de sus viviendas muchas más del mercado al que no pueden acceder

en gran medida ese pequeño porcentaje de personas que terminan ocupando una casa que no es suya algunas de ellas digo

que el sistema no proporciona no consigue proporcionar y ese

que hay debajo y eso es lo que merece primeramente la atención tanto aquí como en cualquier otro lugar en realidad se le ha dicho ya el estado español está otra vez en números

y usted no puede separar el tema usted no puede decir que viene a aquí a hablar de unas cuestiones delictivas que no tienen nada que ver con la cuestión de la vivienda con el problema de la vivienda

estrecha y principalmente vinculada a la expulsión del mercado de amplias capas de nuestra sociedad y el perfil que usted ha dibujado no es correcto es una gran mentira sobre la que están montando todo esto usted ha dibujado un perfil de delincuente mafioso vamos a dejarlo ahí en dos palabras pero resulta que los perfiles de la ocupación son muy diferentes y algún dato se ha dado ya

es la falta de recursos el setenta por ciento de la ocupación proviene de familias

menores a su cargo el sesenta por ciento han pedido

ese es el perfil de la persona que está ocupando en el estado español pero no solo eso sino que están ocupando viviendas que en el ochenta y dos por ciento de los casos

o bien fondos de inversión muchas veces de fondos de inversión buitre entonces según ustedes

las dos cosas que traen aquí lo que hay que hacer es combatir a las personas que son expulsadas del mercado por cometer un atentado y hay que cambiar un montón de leyes para que vayan a la cárcel por lo que veo

es la cárcel y además impidiendo el empadronamiento a muchas personas que es la base sobre la que ejercitar la mayoría de los derechos

ustedes en su propuesta a todas luces inconstitucional pretenden cambiar como ya lo ha dicho seis leyes hasta seis leyes para meter esas

la ley de enjuiciamiento civil que acaba de ser modificada y ahora hablo de ello la ley sobre

la ley de bases de régimen local para poder dejar sin empadronamiento a miles de personas el código penal

y la ley de enjuiciamiento criminal para que se pueda mandar a la cárcel a miles de personas esta es su solución habitacional de emergencia y

vienen a remachar algo que ya viene de lejos y algo que quedó muy empeorado a raíz de la aprobación de la modificación de la ley de enjuiciamiento

que estaría muy bien que el pnv bajara y explicara por qué voto a favor de esa ley por cierto la ley

en esa ley de alguna manera implícitamente se reconocía lo que yo estoy diciendo

como consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica

en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión

así empieza la modificación anti ocupación ilegal de viviendas es curioso que empiece así y dice después de forma casi simultánea han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada y aquí es muy curioso porque lo desvincula dice y en la mayor parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad lo cual es una mentira flagrante pues bien

y lo que hicieron fue dar una solución exprés para que

y sin embargo se olvidaron de dos cosas muy importantes una es que no daban soluciones habitacionales a las personas y familias en situación de vulnerabilidad y lo más que hacen es pedir

para que si hay personas que están ocupando que es un reconocimiento implícito que las personas vulnerables son las que están ocupando

para que puedan entrar en marcha los servicios sociales y demás es decir lo que hacen es darle alta velocidad al desahucio convirtiéndolo en desahucio exprés y permitir que vengan en burro y desde muy lejos

que están en vulnerabilidad pero esta ley

y el problema era como también se ha mencionado que quedaban fuera de estas posibles soluciones es decir incluía a los propietarios particulares incluía incluía a las administraciones pero quedaban fuera lo que para ustedes es el grueso del problema que es decir la mayoría de las viviendas

pertenecen a los bancos y a los fondos de inversión que quedaban fuera de esta posibilidad de desahucio exprés

en unos veinte días evidentemente lo que ustedes hacen es venir a remachar a generar una alarma una tensión exagerada acerca del tema que nos ocupa y lo que hacen de paso es meter en el artículo dos de su ley la clave de todo esto y es que amplían la posibilidad de desahuciar exprés

en doce horas todas las viviendas incluidas las que pertenecen a los fondos de inversión y a los grandes bancos con lo cual

como las personas que son como los agentes que son la gente que lo que viene a garantizar no es el derecho

el derecho subjetivo a la vivienda que tenemos establecido aquí por ley sino lo que vienen hacer es garantizar el derecho

para que pueda desahuciar en doce horas con una patada en la puerta a personas que tienen necesidades

ha venido siendo sencillamente irrelevante eta nik

gracias señora presidenta pues hay una frase hecha que dice vivir para ver y hay que vivir para ver porque señor martínez usted habla de mítines de mítines cuando usted aquí vamos le ha faltado ponerse ahí en medio en la banquetilla empezar con el cartel de podemos detrás y hacer aspavientos porque solo le ha faltado eso para el mitin se ha utilizado un término que mire yo que llevo ya un tiempito en política

que es lo de la criminalización de la pobreza lo utilizan siempre

estamos criminalizando la pobreza que pedimos que se acabe con la ocupación ilegal estamos criminalizando la pobreza porque la defensa de los derechos

exclusivamente y usted dice que no me preocupa la vivienda claro que me preocupa usted ha buscado mi apoyo en iniciativas que ha presentado aquí

de alquiler para el desarrollo de los decretos usted y eh bildu y hemos hablado es que aquí me dice que no le he llamado cómo

usted vuelve a presentar esa iniciativa y probablemente yo presentaría enmiendas y podríamos llegar a un acuerdo o se la aprobaría directamente

pero son dos cuestiones diferentes y lo que no se puede decir es que porque yo hablo de la ocupación ilegal que he defendido siempre que es un delito y que cuando aquí en una comisión

a considerar poco menos que los delincuentes eran los propietarios que querían recuperar un inmueble así se lo hice ver no por mandato de nadie sino porque lo creo firmemente y usted habla de que el domicilio es inviolable claro cuando es un domicilio pero qué ocurre que una persona ocupa ilegalmente una vivienda

y nada tiene que decir una institución pública que sea propietaria de esa vivienda o el particular

se coge se instala y desde ese instante ya haya accedido como haya accedido es una vivienda es su vivienda precisamente de lo que se trata

ese domicilio sí es inviolable tal y como establece la constitución y me dice que porqué lo pido aquí bueno pues porque esa ley afecta a leyes

que se tienen que modificar en el congreso de los diputados

la ocupación ilegal es la solución habitacional no vamos a hacer ninguna exigencia en ese caso

o a los ayuntamientos de que den solución a las personas que están en una situación de exclusión y a las que las instituciones le tienen que garantizar ese derecho a la vivienda no simplemente les décimos ocupen ustedes ilegalmente y ya está

al partido socialista bueno al final también ha dado un pequeño

de que no hay que criminalizar la ocupación y que hay que buscar alternativas habitacionales pues de eso se trata ustedes tienen la responsabilidad en este momento en el gobierno vasco de intentar que nadie se tenga que ver abocados a ocupar ilegalmente una vivienda porque si según usted

habitacional ustedes son los responsables de garantizarle de manera legal esa solución habitacional a usted

le agradezco el tono con relación a si son inconstitucionales o no yo creo que ya sobra el tribunal constitucional en españa porque ustedes en esta cámara todos los grupos

en determinadores de lo que es constitucional oír a alguien de bildu defender la constitución y

vivir para ver pero vamos yo aquí evidentemente he dado pinceladas de lo que sería la ley de lo que las medidas

específicamente y si ustedes tienen tanta duda en caso de que llegase a aprobarse oiga

interponga un recurso de inconstitucionalidad de una ley española y que sea

ya le digo que gracia por lo menos la va a hacer pero ya le digo que le agradezco el tono mire al partido nacionalista vasco

vamos totalmente de no me meto en el fondo a ver si me voy a tener que mojar a ver si voy a tener que decir qué me parece la ocupación ilegal

aquí para que se diga allí porque allí es donde se tienen que modificar esas leyes me alegro que hayan aprendido algo que ya se puede instar a los grupos políticos en esta cámara

otras iniciativas que el partido popular ha presentado

y no se refieren al fondo porque claro a ver si se tienen que mojar qué les parece la ocupación ilegal porque qué le parece al señor urtaran

qué hace mirar para otro lado en un edificio que el mismo ayuntamiento ha dicho que está en riesgo estructural

si sucede algo a los que están dentro el responsable va a ser el ayuntamiento y no hace nada mira para otro lado no hace nada el señor urtaran cuando se le pone una señora delante y le dice que tiene un listado de todas las viviendas públicas que están sin ocupar

y no hace nada y mira para otro lado y aquí aquí lo que se trata es de poner medidas que hay que decidirlas allí

y habrá que decir que se decidan para acabar con esa ocupación ilegal para tener instrumentos para acabar con la ocupación ilegal porque

cuando esa ocupación no se hace porque no se tienen recursos porque esa es la solución darles legalmente una vivienda no mirar para otro lado cuando ocupan una vivienda y a los que la ocupan para otro tipo que los existen y si no vayan a bilbao

y vean para que se ocupan muchas de las casas y qué opinan los vecinos amaitu

con ello lo que pasa que usted prefiere y ya le digo mirar para otro lado y no pronunciarse sobre la ocupación ilegal
y por último ez ez mesedez hurrengo bueltan por último
me ha hecho también mucha gracia eh bildu que diga amaitu mesedez que tiene que el gobierno de españa dar soluciones a las viviendas pero no quieren ustedes ser independientes también el gobierno de españa tiene que dar solución a las viviendas

ez ez lasai bi minutu señora llanos léase su iniciativa y lo que dice en madrid

criminal ya fue reformada y habla de los propietarios particulares y da cinco días lo que usted está proponiendo es un estado policial con lo cual en veinticuatro horas se puede hacer un desalojo sin autorización judicial se lo hemos explicado yo mismo quizá mal el señor andueza después también

punto los particulares están protegidos cinco días tampoco creo que sea

usted ha querido dejar de lado es toda referencia a los fondos buitres no ha hecho ni una referencia veintidós mil viviendas por lo menos ni una sola referencia

el verdadero carácter de su iniciativa lejos de defender los derechos de las personas individuales que pueden tener una propiedad y he repasado las iniciativas que usted ha realizado y sí ha realizado una serie de preguntas y solicitudes de información pero ni una sola iniciativa legislativa en materia de vivienda en esta legislatura ni una

digo por lo que usted ha dicho de que el partido popular se va a poner

esta legislatura y como hemos tenido una novedad por parte del señor andueza se ha estrenado hoy como crítico

tenía una poesía porque bueno aprovechando un poco el día y pido perdón a la cámara y pido perdón a rafael alberti también por recitar tan mal lo que

hizo una poesía que se llamaba desahucio ángeles malos o buenos que no sé

sola sin muebles y sin alcobas deshabitada de rondón

láminas humedad cadenas gritos

te pregunto cuando abandonas la casa dime qué ángeles malos crueles quieren de nuevo alquilarla dímelo

eskerrik asko mahaiburu andrea pues oiga le ha dado gusto literario

de otra manera señora llanos hablaba usted de

y no creo que en mi última parte del discurso haya dado ningún mitin le he puesto encima de la mesa las medidas las herramientas que tiene este gobierno

que pueden tener algunos ciudadanos y ciudadanas para acceder a una vivienda digna se lo he puesto encima de la mesa y eso no creo que sea

sino relatar desde la máxima objetividad la labor que está realizando este gobierno

actúen con responsabilidad pues precisamente eso es lo que estamos haciendo probablemente por eso esta sea una de las comunidades autónomas con menor

de todo el estado español de toda españa por tanto algo tendrá que ver también este gobierno en que esa realidad sea una realidad también positiva para esta comunidad

yo creo que gracias a la ley que tenemos ya encima de la mesa aprobada en esta comunidad autónoma

muchas acciones para paliar ese problema y estoy convencido que en breve tendremos también la posibilidad de tener más herramientas legales para poner en marcha políticas que las políticas de vivienda en alquiler social que ya está poniendo en marcha a través de convenios a través de medidas a través de sus políticas este gobierno y esto lo enlazo con lo que ha dicho el señor otero

en otras ocasiones cuando hemos abordado temas relativos a vivienda que desde luego los primeros interesados en tener esos decretos lo antes posible son los propios miembros del gobierno porque eso les va a permitir

o reforzar políticas que ya están en marcha claro lógicamente las prisas bajo nuestro punto de vista son malas consejeras y lo que nosotros queremos es tener esos decretos con la máxima seguridad jurídica posible para qué para que luego por ejemplo no lleguen los señores del partido popular como hicieron

de la ley de vivienda acordada entre ustedes y nosotros y le metan un recurso de constitucionalidad y tengamos esos decretos parados pues porque a estos señores se les ha metido en la cabeza que eso no tiene garantías jurídicas suficientes las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo con la máxima

con la garantía jurídica de que lo que se apruebe cumple con todos los requisitos legales habidos

entre otras cosas no solo fortalecer algunas políticas sino hacer un uso responsable desde luego un uso social

el viceconsejero el señor jáuregui poco más señor martínez afortunadamente el desahucio del que usted hablaba ha sido paralizado entre otras cosas gracias a la acción

el partido socialista gracias a las juntas generales en las que la mesa y en las que el propio grupo juntero del partido socialista también ha intervenido y lógicamente también

el gobierno vasco por tanto nuestro compromiso sigue ahí siempre

gustado es que ustedes precisamente hubieran votado a favor de la ley que el partido socialista obrero español que al gobierno

para precisamente poder paliar algunos déficits que arrastramos de la época del gobierno del partido popular

sesión en la que debatimos esta cuestión ya le dije que gracias al no del grupo parlamentario

se evitaron por desgracia que muchos españoles contaran con unos beneficios que creo que les hubiera venido bien y hoy como estamos hablando

cuando un gobierno socialista vuelva a llevar una iniciativa de ese tipo

y voten a favor para que esas cosas no vuelvan a ocurrir eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

de vivienda social sin resolver hace falta triplicar el parque de

y usted me dice que están haciendo las cosas bien hechas a su paso y tal yo más bien diría que es complicado llevar adelante una política de vivienda avanzada como socio de gobierno que votó en contra de la ley y que más bien tiene el freno de mano un poquito levantado entonces

en cualquier caso les animo a que se den toda la prisa posible

muy grave lo que están haciendo ustedes ustedes en la ley que proponen

en la exposición de motivos etcétera a mí no tanto porque me preocupe demasiado la constitución española sino porque al final ustedes traen aquí a debate

ya veremos en madrid y al final lo que están haciendo son

ya se le ha dicho con el tema de la inviolabilidad del domicilio que es algo que está sujeto a protección digamos ustedes es muy curioso lo que quieren hacer es desvincular la posibilidad de considerarse domicilio

inviolabilidad en ese domicilio a una persona que está ocupando y para ello el motivo que argumentan es que

del domicilio es una cuestión amplia tiene unas limitaciones sabe cuál es el ejemplo que ponen ustedes la celda de la prisión ustedes dicen que la inviolabilidad del domicilio está limitada por ejemplo cuando se trata de una persona reclusa a eso es a lo que ustedes están intentando equiparar la ocupación

ustedes más le voy a decir usted dice que

en alguna comparecencia aquí se ha hablado como que parece que la persona

recuperar una vivienda pues podría ser se puede ocupar y delinquir y se puede recuperar y delinquir evidentemente depende si uno se sujeta a los procedimientos o no se sujeta a los procedimientos

porque aquí alrededor de la vivienda usted solo habla de una mafia de aquellas personas que con fines lucrativos están ocupando bloques de vivienda en madrid tal en otros lados pero aquí hay más mafias a poco que se haya mirado esto aquí hay más mafias

que es unas personas que actúan alegalmente que intentan desocupar fuera de los procedimientos y fuera de la legalidad entonces se puede ser dueño y se puede delinquir

terminar porque ahora hablo un poquito de la tercera mafia que creo que es la que es la madre del cordero la que está detrás de todo esto

ustedes creo que ustedes son los primeros impulsores de la ocupación

consenso y que yo creo hasta incluso usted podría entrar en ese consenso que la cuestión de la ocupación

de vivienda efectiva que haga de la vivienda que tenga una función social y que se ejecute ese derecho en este caso aquí subjetivo a la vivienda

lo que han hecho es impedir que ese camino se pudiera recorrer ustedes empezaron rechazando con su rodillo el millón y medio de firmas con que vino avalada la ley de la pah de la plataforma de afectados de la hipoteca ustedes

unidos podemos ustedes votaron en contra de la ley vasca de vivienda

presentaron el recurso ante el constitucional y ustedes se han mostrado todavía no se ha votado pero se han mostrado en contra del último decreto

es decir si a todo aquello que está intentando dar una solución habitacional a los colectivos más vulnerables ustedes se ponen en contra

lo que están actuando es en favor de otros intereses y

a la última de las mafias porque esto es una cuestión que viene de largo recorrido esto

si ha habido después del estallido de la crisis inmobiliaria ha habido

que es la base es el humus sobre que se está nutriendo la ocupación

por planteamientos políticos que vienen de su partido y desde hace mucho tiempo o está olvidando

que se mezcló con la burbuja de crédito que aquello acabó como acabó

con una pauperización generalizada con una precarización de la vida

y que detrás de eso si usted quiere mirar muestras o quiere perseguir muestras de mafia no tiene más

por las cárceles de todo el estado español donde están decenas y van a seguir estando cientos de personas vinculadas directa o indirectamente con su partido no entiende que son esas las mafias que principalmente han provocado los problemas que han venido después mire en su casa

la problemática de la ocupación eskerrik asko otero jauna

llanos andreari erantzuteko me ha tachado usted de ambigua y para nada era mi intención desde luego ser ambigua y de hecho cuando nos tenemos que posicionar sobre cualquier cuestión lo hacemos

que entiendo que este debate no se debería de suscitar aquí no al menos en la forma en la que usted lo ha traído si verdaderamente les preocupa el problema de la ocupación ilegal de las viviendas en euskadi que es para lo que venimos aquí a hablar de los temas que nos ocupan en euskadi pues traiga una proposición no de ley o la forma que usted estime para hablar de ello

y sobre la ocupación pues ya se manifestó el grupo parlamentario del pnv en madrid cuando se aprobó la ley cinco barra dos mil dieciocho que se ha mencionado sobre la ocupación y desde luego si lo que ustedes pretenden es ampliar los supuestos

a las viviendas que puedan ser propiedad de los fondos de inversión o de los bancos

sería contraria si es que quiere que le marque de alguna manera nuestra oposición también en esa cuestión pero de ambigüedad

elkarrekin podemos ha presentado esta iniciativa sobre el acceso real a la justicia de quienes denuncian violencias machistas y hemos logrado un acuerdo amplio trabajamos desde que llegamos a este parlamento para dar respuestas a muchos de los retos

y en esta ocasión y una vez más desde que llegamos aquí como decía ponemos en el centro del debate

ponemos el acento en las revictimizaciones que sufren muchas mujeres cuando acuden a la justicia hoy una vez más podemos hablar de acuerdo

amplio y ambicioso en un tema tan importante como es el acceso real a la justicia para quienes denuncian violencias machistas eskerrik asko a todas porque sin duda es un gran acuerdo desgraciadamente asistimos a un aumento considerable de las denuncias por violencias machistas

y también por violencia ejercida por desconocidos este aumento lo corroboran los datos del poder judicial y de la fiscalía euskadi registró a lo largo de dos mil dieciocho un total de cinco mil seiscientos cuarenta denuncias por violencia de género lo que supone un crecimiento

esto supone más o menos que cada hora y media una mujer denuncia violencias machistas al menos

porque todas las que estamos aquí presentes sabemos que eso no es cierto ya que por cada mujer que denuncia hay muchas otras que no lo hacen así que

en euskadi seguimos con unas instituciones que deberían estar preparadas no solo para sensibilizar concienciar también para dar una respuesta adecuada y a día de hoy seguimos sin dar una respuesta adecuada esta iniciativa significa un gran paso

víctimas de violencias machistas está claro que esto se va a revertir si se cumple esta iniciativa

como decía creo que es muy importante este acuerdo porque ensancha el camino para que las instituciones en este caso la institución de justicia mejore la atención a las víctimas de violencias machistas con medidas de corto medio y largo alcance medidas que buscan

y también que buscan cambios más de fondo más profundos todo esto es lo que traemos hoy con este acuerdo en primer lugar se solicita al gobierno vasco a revisar los protocolos de coordinación entre las policías

para unificar criterios y mejorar actuaciones de las administraciones en la atención a violencias machistas y con esos protocolos que

así como trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales y personas que intervienen en casos de violencias machistas en segundo lugar que el gobierno vasco proporcione

formación específica en violencias machistas y de género a todo el personal que trabaja en los juzgados es decir fiscalía forenses abogacía psicólogas trabajadoras sociales personal de justicia etcétera con el fin de evitar la revictimización

real a la justicia como todas saben el ararteko emakunde trabajadoras de la judicatura fiscales etcétera han señalado en numerosas ocasiones como preocupante la atención que reciben en nuestros juzgados los niños y niñas que comparecen ante ellos

víctimas e indican entre los aspectos a mejorar

la necesidad de mejorar la formación de dar una formación concreta cuyos contenidos verso sobre la violencia de género y menores con exposición a la violencia

y que esta se imparta a todos los colectivos profesionales así que con el cumplimiento de este punto garantizaremos una mayor sensibilización y mejor atención a las víctimas

en el que se encuentran muchas mujeres con personas traductoras ya que en ocasiones no traducen literalmente lo que la persona agredida cuenta porque no tiene una formación en violencias machistas y cuestionan sus relatos así que con el tercer punto que se aprueba en esta iniciativa

se incluya la condición de la especialización y formación obligatoria en materia de género violencias machistas e interculturalidad para la prestación del servicio del juzgado de violencia

en cuarto lugar el gobierno vasco dotará a los servicios de atención a víctimas de violencias machistas que dependan de él de todas las herramientas que sean necesarias para que toda la

y proteja la intimidad de las mujeres con diversidad funcional en quinto lugar se realizará una evaluación de las instalaciones de atención a víctimas de violencias y juzgados mixtos durante dos mil diecinueve y que una vez realizado el informe se tomarán las medidas necesarias para garantizar la no

niñas niños y adolescentes víctimas de esta forma vamos a acabar de una vez por todas con esos espacios donde coinciden las víctimas

agresores espacios donde las y los menores tienen que escuchar lloros y experiencias de otras violencias de otras mujeres

donde no hay intimidad y no se respeta la ley de protección de datos sin duda

una evaluación estudio de las oficinas del servicio de asistencia a la víctima

de que estas oficinas se ubiquen cercanas a los juzgados y la necesidad de que este servicio cuente siempre con profesionales en psicología y trabajo

en séptimo lugar se implantará el servicio de acompañamiento integral dentro del redimensionamiento del servicio de atención a la víctima en octavo lugar se resalta la importancia de seguir trabajando de la consecución de una mayor

al objeto de ampliar y reforzar todas las medidas necesarias en orden a garantizar a las mujeres y menores víctimas de violencia machista una atención integral y evitar

en noveno lugar se culminará con el proceso de revisión y actualización del convenio para la asistencia jurídica inmediata a personas víctimas de violencia sobre la mujer de violencia doméstica y de agresiones sexuales en la comunidad autónoma del país vasco con los colegios

históricos y por último se solicita que se cumplan en su totalidad los acuerdos alcanzados a partir de la moción debatida el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete

en el plazo máximo de seis meses el plan para mejorar el acceso a la justicia que se acordó por unanimidad así como dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la comisión de trabajo y justicia el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete a partir de la iniciativa relativa a los juzgados de violencia hacia las mujeres los acuerdos siempre los celebramos pero en esta ocasión estamos especialmente contentas contestas porque a pesar de las diferencias hemos llegado a un acuerdo muy importante

de violencias machistas elkarrekin podemos desde que llegó a este parlamento trabaja siempre con el objetivo de elaborar y aprobar políticas públicas feministas que se construyan mano a mano sobre la base de una escucha activa y diálogo

hay mucho de eso y refleja mucho de los desafíos que se están planteando desde la agenda

a la ciudadanía y hacer posibles los derechos de todas las mujeres y también cómo no en la justicia el acuerdo de hoy es una muestra de cómo hacer política desde el diálogo y consiguiendo acuerdos de consenso fuera de focos y titulares que luego se quedan en eso titulares esperamos que este acuerdo no se quede en el cajón del olvido y que se cumpla íntegramente sé que la intención de todas las mujeres que hemos participado e intervenido en esta iniciativa y en este consenso así lo quieren que se cumpla

quien adquiere el compromiso de ponerlo en funcionamiento las mujeres que deciden

no pueden continuar siendo revictimizadas por la institución que tiene la responsabilidad de hacer justicia y esta iniciativa significa un gran avance
hacia esa justicia menos patriarcal y más justa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana

adibide oso garbiak la violencia machista no cesa y cuesta la vida a miles de mujeres en todo el mundo y ha sido

algo que todo el mundo ve y ha obligado a las sociedades a dotarse de una serie de elementos para erradicarla evitarla o paliar sus efectos y la verdad es que lo que hoy nos trae aquí es que tenemos que seguir reflexionando sobre si lo que hemos puesto en marcha sirve ha sido suficiente

el éxito que pensamos que debería de tener cuando lo ponemos en práctica porque la lacra continúa la violencia machista sigue por eso me parece importante

hagamos esa reflexión y propongamos revisar los protocolos

propongamos mayor coordinación y propongamos formación porque esto nos va a permitir mejorar para acabar con ello

contra la violencia machista es mayor ba nik uste uste dut hori ez dela nahikoa

y se han cambiado tipos de delito pero a pesar de todo

con una proposición de ley reiterando el cumplimiento de otras que hayamos acordado y que todavía están sin terminar a juicio de euskal herria bildu y lo hemos dicho muchas veces todo lo que concierne a la violencia machista debe considerarse cuestión de gobierno cuando euskal herria bildu planteaba

a esto debe de ser central debe de ser una prioridad y la pregunta que nos hacemos es si esto es así en el gobierno vasco si es una prioridad y si esto es así porque

en ponerse en marcha y esto me preocupa y me preocupa mucho porque a veces me hace pensar que tenemos que darles unas vueltas más a nuestra labor

verdaderamente la eficacia de lo que acordamos y si volver a reiterar las cosas es eficaz lo hacemos no tengo ninguna duda pero creo que en un tema de esta naturaleza y con este calibre

hay que insistir más e igual en algún momento

medidas de otra naturaleza no solamente reiterar los acuerdos sino hacer algún otro tipo de propuestas para que verdaderamente tomen forma porque

makina jarrita dago baina beste gauza guztiak berdin berdin daudela la sociedad se alarma ante la violencia machista y esta violencia aparte de ser una vulneración de derechos humanos fundamentales

por ello y así lo entendemos y así lo recoge la iniciativa hay que poner en marcha planes de acción hacer que la justicia sea accesible a las víctimas coordinar las acciones policiales y judiciales formar

que trabajan en la justicia y sobre todo dotarnos de recursos adecuados invertir en igualdad de género es importante pero también

y voy a terminar con una frase de la furia de la cantante rapera nerea nerea dice en una canción

un ejercicio de pedagogía y un ejercicio de empoderamiento y cuando nerea dice quisiera vivir

quiere vivir sin agresiones quiere vivir en un mundo donde sus derechos sean respetados nosotras pensamos eso mismo y para poder hacer esto

poner en marcha estas medidas pero no solo ponerlas en marcha sino conseguir su ejecución por eso damos apoyo a la iniciativa por eso estamos contentas como decía eukene por el resultado y ahora esperamos que el gobierno y la

de manera inmediata lo más rápidamente posible antes de que tengamos que volver a aquí con una iniciativa parecida besterik ez eskerrik asko goirizelaia

yo quiero iniciar mi intervención yo soy menos poética estamos en el día de la poesía la literatura entresacamos citas de autores importantes raperos de fama y tal yo ayer pensando cómo volvíamos a intervenir sobre este tema sin repetir el tema de datos que seguramente se iba a hacer o algunas otras cuestiones que ya habíamos

que ya se han realizado durante esta legislatura en esta cámara cuando ya hemos tratado esta materia y que yo creo que refleja cuestiones importantes y

sino también de forma decidida y eficaz en el terreno educativo cultural y social creemos que educación y prevención son claves para la erradicación de esta lacra social

prestar este servicio prestarlo bien y prestarlo partiendo del interés y de los derechos de las víctimas y no al revés

partiendo del interés de las víctimas porque es para satisfacer ese interés

también vamos a trabajar e insistir para que el plan tenga asignación presupuestaria porque si no está soportado por una asignación presupuestaria pues ningún plan se puede llevar a cabo también hablábamos de la interseccionalidad son fragmentos que discursos que seguramente quienes los han realizado se han identificado con ellos pero que podría ser de cualquiera de las portavoces que intervenimos en esta

machista desde la perspectiva de las mujeres víctimas el discurso es compartido y sabemos y verbalizamos que tan importante como es el contenido de lo que hoy acordamos

es también fundamental yo agradezco el tono que se ha utilizado de forma previa por las portavoces que han intervenido para

esta materia es un diagnóstico y un compromiso compartido para la promoción activa de las políticas de igualdad prevención detección atención protección y sensibilización social aspectos todos que tienen que tener

una presencia transversal en las políticas públicas que desarrolla el gobierno vasco es bajo este prisma y no desde otro desde que se están implementando las políticas del departamento de justicia en la lucha contra la violencia machista

donde se marca el acuerdo transaccional que hemos podido firmar los grupos socialistas nacionalistas elkarrekin podemos y eh bildu y que seguramente apoye también posteriormente el partido popular y en el que reincidimos sí es cierto reincidimos en la necesidad de continuar avanzando en determinadas cuestiones

o modificando eso tiene que ver con las políticas de evaluación de los servicios que se ponen en marcha si nosotros lo compartimos

hemos centrado las ha relatado la portavoz de elkarrekin podemos pero yo voy a destacar algunas cuestiones

transaccional instamos a que se revisen los protocolos de coordinación entre las policías locales y la ertzaintza con la administración de justicia como todas conocemos este trabajo se realiza

de mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales y también en las comisiones que se han vuelto a poner en marcha de coordinación contra violencia de género

el pacto de estado contra la violencia de genero que la revisión y la mejora de las herramientas

que atraviesa la actuación del gobierno vasco y que alguien se lo preguntaba yo creo que lo pudimos comprobar muy recientemente en una visita que realizamos los grupos parlamentarios a la ertzain etxea de erandio hace muy poquitos días allí pudimos comprobar de primera mano

cómo se desarrolla cómo se analiza y cómo se implementan mejoras en las herramientas de evaluación y de protección

la revictimización de las mujeres que sufren la violencia machista creo poder decir sin equivocarme

pues avalan que la lucha contra la violencia de género es una ocupación y es una preocupación del gobierno vasco en su conjunto como es una ocupación y una preocupación

y coincidimos que tenemos que seguir insistiendo es en la formación específica en materia de violencia de género de todo el personal que trabaja en los juzgados

en la conformación de la oferta de cursos no ya desde dos mil dieciocho

orientación y de una formación orientada al conocimiento jurídico procesal de la materia hacia un conocimiento transversal de la violencia de género del trato con las víctimas y con los agresores así como la afección emocional

de cómo conseguimos el compromiso de esa formación por parte de los funcionarios que también tienen

que tendremos que ir resolviendo porque si hacemos una oferta que después no es asumida por parte del personal pues tenemos también ahí alguna disfunción por eso creemos que

entre todos los operadores de la justicia y ahí encontramos a la judicatura a la fiscalía a los abogados

etcétera sabemos que es una formación que ya se posibilita desde el departamento de justicia por diversas vías acordadas con jueces o con judicatura o con los colegios

con la formación de quienes intervienen en el proceso judicial y ese compromiso tiene que ser bidireccional de nada sirve que solamente haya una oferta si no hay un compromiso también por parte del resto de operadores a veces lo hacemos con el tema de la obligatoriedad los abogados y los procuradores lo tenemos muy claro porque para poder estar en el turno de violencia de género tenemos una formación inicial y una continua que

también incidimos y yo creo que es importante en un servicio que es fundamental para una atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia machista y es el servicio de atención a la víctima

en que es necesaria una nueva ubicación de este servicio es un traslado en el que ya se está trabajando desde hace cierto tiempo por el departamento de trabajo y justicia y que nos va a permitir dos cosas que para nosotros también son importantes por un lado

el servicio de atención a la víctima y el servicio vasco de gestión de penas y por otro lado va a permitir la ampliación de ese segundo servicio para pasar de veinticinco a cuarenta personas en la plantilla

para que se puedan implementar las mejoras que se consideran adecuadas para una mejor atención de mujeres niñas niños y adolescentes víctimas de violencia machista que se apliquen en esa nueva aplicación que se les tiene que dar a ese servicio ahora bien

que tiene que ser el prisma de servicio público y no desde el prisma de reivindicaciones o presiones laborales que puedan orillar ese interés fundamental que nos tiene que mover que es la asistencia y la atención que nos debe guiar en esta actuación y la prestación de este servicio

ese el prisma central de nuestra actuación solicitamos la implantación del servicio de acompañamiento integral

pues pasa un tiempo que a veces desespera pero es cierto que el recorrido y el camino que llevamos creemos que es el camino correcto con este servicio lo que se pretende es que la persona víctima que tiene que acudir al juzgado lo haga en las mejores condiciones posibles para evitar la victimización secundaria

el proceso con garantías con una información pormenorizada con una asistencia con una comunicación con una socialización de la espera que se produce con una gestión de los protocolos de acceso a los juzgados y con una resolución de los imprevistos con una persona de referencia es decir

y por ello es por lo que queremos avanzar dentro de esta proposición en el concepto del acompañamiento terapéutico que ya hemos hablado también

hemos hablado de coordinación interinstitucional de trabajo en red de atención integral de asistencia jurídica inmediata de adecuación de los espacios de los juzgados

fundamentalmente porque el edificio es una realidad física muy tozuda sí que es cierto que tendremos oportunidad con el traslado de la fiscalía a

tenemos pero claro tiene que darse primero un paso y luego otro y luego hay que conseguir una cosa que por las comparecencias que hemos tenido en la casa sabemos que tiene su dificultad que es lograr el consenso de todos los afectados

no solamente representantes de trabajadores también de la judicatura que tiene también sus cuestiones también de fiscalía y de otro tipo de operadores que también intervienen ahí pero bueno la cuestión es

si no tendríamos en este momento esa previsión de traslado de la fiscalía no tendríamos esa oportunidad de replantearnos o de redimensionar los espacios que actualmente ocupa por ejemplo el juzgado de violencia de género yo creo que el rumbo es firme

creo que el rumbo es compartido y es algo que no debemos olvidar ponerlo en valor lo han hecho las portavoces que me han precedido lo he hecho yo y espero que lo hagan también quienes me precedan

una vez más la cuestión de violencia machista en este parlamento se saca por unanimidad gracias el esfuerzo de todas
por haber conseguido que hoy también consigamos un acuerdo así eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

andrea sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi la asamblea general de las naciones unidas manifestaba en mil novecientos noventa y tres la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las libertades y pone en peligro los derechos humanos de las mujeres la libertad individual y la integridad física

no obstante sí que sería interesante hacer una reflexión sobre diferentes factores

que solo se denuncia un pequeño porcentaje de los casos algunas mujeres nunca denuncian a sus agresores en muchos casos es consecuencia de la normalización de la violencia

en otros casos aun siendo consciente de la victimización no se denuncia por miedo también hay mujeres que acuden a vías no oficiales o no formales como pueden ser la ayuda familiar o asociaciones de mujeres en euskadi en los últimos diez años el número de víctimas de violencia machista

si comparamos datos de dos mil ocho y dos mil dieciocho cuatro mil ciento setenta y uno mujeres en dos mil ocho y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro mujeres en dos mil dieciocho agresiones machistas lo cual supone entre trece y once denuncias al día desde dos mil catorce emakunde recoge por separado el número de denuncias así como el de víctimas ya que una misma mujer puede denunciar varias veces a su agresor en dos mil dieciocho por ejemplo se registramos cinco mil trescientos quince denuncias como

la señora arana por violencias machistas pero se contabilizaron cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro víctimas hay por tanto más de una denuncia presentada por la misma mujer

victimizaciones y trescientos ochenta y cinco víctimas por tanto son

los factores a tener en cuento y desde luego son datos escalofriantes y aun así

euskadi fue la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de víctimas de violencia de género

con una tasa de cuarenta y nueve coma nueve se sitúa a más de dieciséis puntos por debajo de la media estatal euskadi tiene un ratio de trece coma once víctimas de maltrato por cada diez mil mujeres por debajo de la media española de diecisiete coma diez

que euskadi y vuelvo a señalar que aun así tenemos que seguir trabajando tenemos mucho camino por delante mucho por hacer

también cabe destacar que con la mayor sensibilización y toma de conciencia por parte de las mujeres también aumentan las denuncias pero por supuesto vuelvo a repetir debemos seguir trabajando para hacer desaparecer de nuestra sociedad la violencia machista

titulares con aportaciones constructivas y dando pasos día a día pasos que a veces pueden ser lentos pero que son necesarios esto es un trabajo y una labor continua erdibidekoa dela eta

las tres comisiones provinciales de la mano de las correspondientes audiencias

personal técnico responsable de los servicios sociales un gran número de profesionales trabajan en todo lo relativo a la mejora de los mecanismos de coordinación

el nueve de enero finalizó el proceso de trabajo de evaluación de los estándares de calidad en la atención de mujeres víctimas de violencia

en colaboración con varias agencias de naciones unidas y que ha servido para identificar los principales retos de futuro las conclusiones de dicho estudio han permitido mejorar la nueva propuesta normativa se va a reforzar y ampliar la actual normativa señora goirizelaia sí es una prioridad para el gobierno vasco

sólidos con marco legal con experiencia en igualdad y con personal técnico especializado y sobre estos cimientos el anteproyecto de ley actualmente en elaboración supondrá un paso más y reforzará las medidas desarrolladas tanto en la atención y prevención ante la violencia contra las mujeres

comparto totalmente estas afirmaciones se trata de un proyecto realmente ambicioso pionero nuevamente en euskadi que recogerá conceptos muy y sobre todo y lo más importante que dotará a nuestra sociedad de nuevas más y mejores herramientas para erradicar la violencia machista zoriontzekoa beraz gaur lortutako

gracias otra vez señora presidenta buenos días de nuevo a todos bien a la

ha empezado con unas palabras de la onu yo voy a empezar con unas palabras que mi compañero el señor ruiz de arbulo dijo en esta misma

aquí se han dado los datos de víctimas y como el bien decía con que existiera una sola una sola víctima

cualquier tipo de violencia sería suficiente para activar todos los mecanismos que durante mucho tiempo hemos ido poniendo y para que no solamente este gobierno sino para que toda la sociedad fije como prioritario como una prioridad la lucha contra la violencia de género para que esta desaparezca de nuestra prensa de nuestra actividad judicial y de pues nuestra vida diaria lamentablemente

es que a pesar de que vamos mejorando y es indudable que vamos mejorando en la propia concepción que la sociedad tiene de la violencia de género no hay más que echar la vista atrás y ver qué conceptos se tenían no hace tanto tiempo y la inadmisibilidad que ahora hay toda la sociedad a este tipo de violencia pero a pesar de todo ello a pesar de que se ponen medios a pesar de que se ponen protocolos no solo no existe una sola víctima sino existen muchas más

ha aumentado en lo que no parece tener fin y aunque como decía la sociedad cada vez nos vamos concienciando más cada vez vamos siendo más conscientes de que es un problema de todos y que nos afecta a todos lamentablemente parece una lacra difícil de erradicar el departamento de justicia

todas las instituciones de euskadi y todas las instituciones del resto de españa todos los partidos políticos y toda la sociedad debemos de estar implicados en esta lucha y lo estamos

pudieron hacer sus aportaciones todos pudieron dar lo mejor de sí para que esta herramienta fundamental contra esta lacra social como decía

avanzar esa lucha porque en ese pacto se contienen muchas medidas en distintos ámbitos es verdad que en otras ocasiones que se ha debatido esta cuestión aquí

más apocalíptica de la situación en euskadi y es verdad que hoy aquí no se ha dado porque es cierto que aunque hay mucho ámbito de mejora también es cierto que se han hecho muchas cosas que son muchos los resortes que son muchos los recursos que son muchas las personas trabajando contra la violencia de género punto sí quiero hacer un inciso es verdad que cuando fuimos a los juzgados

nos hicieron reivindicaciones que puede parecer reivindicaciones

esas reivindicaciones afectan al nivel y a la calidad de la justicia que se suministra

a las víctimas de violencia de género que es de lo que estamos tratando hoy aquí pero como decía son muchos en euskadi los que están trabajando

efectivamente y tal y como ha dicho la señora castelo el viernes trabaja mucho en este sentido hace un estudio individualizado de cada víctima un seguimiento personalizado

las veinticuatro horas existen muchos funcionarios muchos magistrados muchos jueces fiscales procuradores y procuradoras abogados y abogadas que cada día trabajan para ello existen muchos psicólogos y psicólogas trabajadores sociales y equipos psicosociales que como digo están

como decía con el desgaste físico porque trabajan muchas horas y con el desgaste emocional que en muchas ocasiones le supone desgaste emocional

las instalaciones que la movilidad en este tipo de tribunales y en este tipo de juzgados sea muy alta por eso decía que las condiciones en las que se ejerce el trabajo no solamente laborales sino también de todo tipo

para evitar esa movilidad que creo que no es buena dicho que existen muchos recursos también

que quedan cosas por hacer y que es verdad que aunque no tenemos la varita mágica desgraciadamente sí que se pueden hacer cosas que no se están haciendo que eran objeto de la iniciativa que hoy se planteaba aquí porque como dice los dos últimos puntos decían de la iniciativa y también de la enmienda que se ha acordado en esta cámara se llegó por unanimidad a dos acuerdos uno el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete y otro el veintinueve de noviembre del mismo año este último es verdad que

aprobamos todo por unanimidad y efectivamente aquellos acuerdos si hubieran tenido cumplimiento aquellos acuerdos tal y como se establecían allí que como digo fueron adoptados por unanimidad muchos de los puntos que hoy se traen aquí no se tenían que haber traído porque

muchos de esos acuerdos que fueron objeto de aquellos acuerdos adoptados por unanimidad

en la comisión de trabajo y justicia y se nos vino a explicar cómo funcionaba el servicio prestado a las víctimas de violencia de género cuál era su calidad

pudimos comprobar o pudimos oír que quedan todavía muchas cosas por hacer que quedan muchas cosas por hacer

por unanimidad porque es importante que nosotros como representantes de los grupos políticos como representantes en definitiva de la sociedad vasca

que dejemos a un lado los peros que podamos tener cada uno de los grupos para poner en común los pros y llegar a ese punto

de manera correcta a las víctimas de violencia de género para aquellas que como bien se decía no son todas porque en muchas ocasiones la denuncia no es fácil para una mujer víctima de violencia de género para aquellas que se deciden dar el paso y denuncian pues que el acceso a la justicia a este tipo de mujeres les sea más fácil de lo que les es en este momento pero yo creo que tan importante como que

y que no tenga una la frustración porque es verdad de que una al final tiene la frustración de que lo que se ha acordado hace

muchas de esas cosas queden todavía por hacer

se lo dijimos a la proponente casi desde el principio la veíamos bien

y apoyar esta iniciativa no quiere decir reconocer

quiero volver a insistir en que se están haciendo muchas cosas y que muchas cosas se están haciendo muy bien pero que se puede hacer más y que se debe hacer más y sobre todo se deben hacer cosas que acordamos que se debieran haber hecho y que todavía

no se han hecho por ejemplo se presentó que es objeto de la iniciativa una enmienda por parte de este grupo

judiciales y la enmienda no se ha empleado en su totalidad para ese objeto por ello

íbamos a votar a favor de la iniciativa original y todavía estamos más contentos de votar

va a suponer que se llega por unanimidad a este tipo de acuerdo y lo íbamos a hacer pues porque estamos de acuerdo con la coordinación es verdad que existe pero probablemente como también se decía aquí hay que revisar lo que se hace y ver si se puede mejorar pues estamos de acuerdo con esa coordinación entre las policías locales la ertzaintza

estamos de acuerdo en mejorar con la formación que se hace pero que creemos que hay que mejorarlo esa formación específica a todo el personal relacionado

para evitar como bien dice la iniciativa esa revictimización o eliminar obstáculos que impidan el acceso a la justicia estamos de acuerdo con la especialización

en la enmienda para que haya una especialización e información en materia de género aquel personal que está destinado a los juzgados de violencia de género estamos de acuerdo con dotar de accesibilidad a los juzgados para que

todas puedan acceder a la justicia cuando se deciden a denunciar y estamos de acuerdo es verdad que es una cosa a largo plazo y que probablemente no se puede hacer pero cuanto antes empecemos antes vamos a terminar con evaluar las instalaciones de atención a las víctimas

las más adecuadas y también con el servicio de acompañamiento integral y con

de todas las instituciones y ese trabajo en red que es imprescindible para poner en marcha esas medidas necesarias

como décimos revisar ese convenio de asistencia jurídica de ese personal tan importante como somos los abogados y abogadas destinados o que cubrimos las asistencia a las víctimas de violencia de género y sobre todo
dar cumplimiento a esos dos acuerdos amaitzen joan como digo algunos

llevarán más tiempo pero cuanto antes empecemos antes acabaremos como décimos y con esto concluyo y no creo que haya lugar a una segunda intervención nos parece

que cuando vengan a esta comisión de nuevo no tengamos que escuchar lo que escuchamos la otra vez sino que nos digan todo lo contrario que el avance ha sido significativo y que la calidad del servicio

creo que es un trabajo en el que debemos estar y creo que estamos todos porque la finalidad de erradicar la violencia de género
nos une a todos muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzunen txandara

muy breve simplemente con la señora llanos solo decir que apocalíptico no sé pero horrible

espacios donde coinciden las víctimas con los presuntos agresores los niños escuchando los relatos tan horribles que se pueden llegar a escuchar ahí pues bueno apocalíptico no sé pero horrible seguro con respecto

que haya menos denuncias con respecto a otras autonomías no garantiza que aquí no se estén dando esas violencias entonces simplemente matizar que ese mensaje puede dar

puede haber no lo sabemos menos violencias machistas y como hay

agresiones machistas que no se denuncian evidentemente no sabemos si en nuestra comunidad autónoma se dan más o menos violencias simplemente era

por matizar la proposición de norma a la que ha hecho mención sin duda será un avance pero será un avance si realmente avanzamos mucho con respecto a lo que hay ahora entre todas logramos un buen acuerdo pero ya sabemos que como toda ley si no se dota de recursos pues se queda en eso en papel

creo que esta iniciativa es un gran paso con respecto a lo que nos atiende hoy para cambiar esa justicia patriarcal

y hace que el acceso a la justicia al menos sea más amable y creo que mejoraremos mucho y que esto es una carrera de fondo y que son medidas a corto medio y largo plazo el ocho de marzo

hoy presentes volvieron a solicitar más recursos y menos fotos y creo que hoy esta iniciativa

en elkarrekin podemos trabajamos a conciencia para conseguir aquello en lo que creemos

que no deja a nadie atrás una euskadi justa participativa igualitaria y democrática

justa inclusiva participativa igualitaria y democrática pues no basta con más mujeres

que todas las leyes iniciativas y planes tengan perspectiva de género

vulneración de derechos humanos y las violencias machistas sean los necesarios para realmente dar una respuesta concreta a todo esto y en cualquier caso sin duda me quedo con este gran acuerdo un paso más

hacia una justicia menos patriarcal y más justa con las víctimas de violencias machistas así que

por lo que hoy se va a aprobar aquí así que eskerrik asko eskerrik asko arana

pero también es cierto que se están adoptando medidas medidas que lógicamente no se ven en

en un recorrido igual de corto o medio plazo me estoy refiriendo y lo escuchamos hace muy poquito en esa comparecencia de los trabajadores de lab

de salud laboral de los juzgados destinados a mejorar las relaciones interprofesionales

de acciones grupales con un objetivo que es trabajar la educación emocional la comunicación no violenta y el liderazgo todo esto que se hace igual de una forma como digo yo más silenciosa o con el compromiso de también la participación activa y de la dedicación que prestan los funcionarios a veces no nos damos cuenta pero está todo por ahí por eso yo me quedo con lo que ha dicho también la señora llanos la señora

arana se hace mucho se hace bien pero hay que hacer mucho más

hay que evaluar hay que mejorar escucha activa y consenso y con eso me quedo hoy unanimidad cuando tratemos este tema eskerrik asko

todos los datos que he aportado son objetivos que pueden gustar más o menos no han sido para nada para dar lugar a ninguna impresión equivocada han sido datos objetivos en cuanto al tema de los recursos

a estas alturas de la película viendo cuál es el compromiso que se ha adquirido solo ya únicamente con todos los trabajos previos a la presentación del proyecto de ley me parece que el compromiso está claro y que los recursos que van a ser necesitados van a estar ahí

a todas por el acuerdo alcanzado me parece muy importante nuevamente un nuevo acuerdo

así se consigue construir y la verdad es que estoy
muy contenta agradecerlo a todas vosotras gracias eskerrik asko arrizabalaga anderea amaitzeko